efectivamente brindamos reconocimiento a las víctimas del franquismo a los luchadores antifascistas sin duda habitualmente y lo haremos más sin embargo me pregunto si les damos la reparación que se merecen me pregunto cómo damos el salto del reconocimiento

la legislación internacional nos da algunas pistas nos ofrece algunas herramientas de cómo dar reparación a las víctimas en este caso del franquismo

segundo derecho a recibir un trato justo que incluya medidas para minimizar los efectos de la vulneración proteger su dignidad

su seguridad tercero derecho a la asistencia material médica social educativa psicológica que sea necesaria cuarto derecho a la restauración y al resarcimiento que comprenderá

y quinto derecho a la indemnización los estados indemnizarán a las víctimas del delito de lesa humanidad que hayan sufrido importantes lesiones corporales o

o a aquellas personas a su cargo a la luz de estas exigencias diría sinceramente que las instituciones todavía tienen un largo recorrido que hacer para traer reparación

restauración indemnización a las víctimas del franquismo y en introducir en la ley estas medidas traíamos una iniciativa que pretendía avanzar en este camino y para eso pedíamos traer un informe previo para que este

sepamos a qué atenernos qué medidas se han puesto en marcha acotar el terreno ver lo que se haya hecho y buscar con qué medidas de reparación deberíamos introducir en la ley por lo que queda por hacer esan bezala erakunde batek modu asko ditu erreparazioa emateko baina nire ustez neurri

ez zaiela eskaintzen han existido iniciativas de indemnización y resarcimiento para las víctimas del franquismo en el pasado no se puede negar

han sido parciales han sido fragmentarias han sido probablemente insuficientes pero lo que no podemos soslayar es que estas medidas se hicieron y que ahora necesitamos complementarlas desarrollarlas y ampliarlas

así fueron los denominados decretos madrazo el decreto doscientos ochenta barra dos mil dos sobre compensación a quienes sufrieron privación de libertad por supuestos

y sus tres modificaciones posteriores en este sentido vino el decreto veintidós barra dos mil seis por el que se establecen disposiciones para compensar económicamente a las personas privadas de libertad incluida la padecida en batallones disciplinarios de soldados trabajadores

autónoma del país vasco todos estos decretos tienen baremos de indemnización todos incorporan tablas de compensación económica

que reconocen a otras víctimas coincidentes en el periodo temporal al que la futura ley de memoria histórica que elevaremos se va a referir y también esas otras leyes para esas otras víctimas

tablas de indemnización lo hace la ley veintinueve barra dos mil once de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo o el reglamento que la desarrolla por decreto seiscientos setenta y uno barra dos mil trece establece valores de indemnización la ley

el gobierno la propuesta el proyecto de ley de memoria histórica no incorpora este tipo de indemnizaciones

precisamente es que no las tenga según el borrador que se nos ha traído el artículo doce habla de medidas de reparación y leemos gogora

analizará como medida de reparación analizará el conjunto de medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas y reconocidas tanto en una normativa estatal como la autonómica

un análisis camuflado como medida de reparación qué texto legal es este qué contenido imperativo

un análisis y después ya se proveerá el carro antes de los bueyes porque haremos previamente el análisis que corresponda y luego

iniciativas vía reglamento no sería al revés primero vamos a valorar en el parlamento vamos a conocer cuál es la situación vamos a darle rango de ley

vamos a ver cuál es la disposición adicional que se invoca se designará una comisión técnica que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley presente un estudio

yo pedía que se avanzara ese informe que se trajera previamente para

instalar esas medidas de reparación en la ley que vamos a debatir en este parlamento más o menos como se hace en otras leyes pero

se va a negar una solicitud tan mínima tan básica como la que estaba realizando el debate entonces se dará después de traer la ley dónde en gogora por qué en el consejo de dirección de gogora

y por qué se lleva después al consejo de dirección de gogora para dejarlo bajo el capricho de gogora tal vez porque la composición

al gobierno y a los partidos que lo sostienen van a traer una ley que se supone debe ofrecer medidas de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo y mutilan su debate en este parlamento para después en otro órgano en otro consejo en otra comisión que tal vez se decida algo

dar un debate sobre una ley y dejar la cuestión crucial de las medidas de reparación para decreto de verdad van a traer una ley para no establecer ni una medida de

más vacía imposible conjunto vacío

itxoinarazi eh bildu trajo una propuesta de ley

y reparación integral de las víctimas del franquismo ustedes señores del pnv nos traen una ley de memoria

se les ha caído por el camino se les han descolgado al menos del título de la ley para luego ver en el articulado que no tienen ninguna forma de reconocimiento y ninguna medida sustantiva o material de reparación

nada sino para obstaculizar el camino de quienes quieren de quienes queremos

una ley traída de mala gana y sin contenidos una ley vacía y sin ninguna ambición

un informe previo de algunos expertos sobre las indemnizaciones hechas y las que convendría hacer solicitábamos ese informe para guiar mejor nuestro debate legislativo la solicitábamos para ahorrar tiempo nada de esto se va a conceder pensábamos que era una iniciativa razonable pero hoy se le va a dar portazo

aunque solo sea para desvelar que realmente ese informe es una excusa y lo que realmente se quiere es hurtar el debate de este parlamento

dirección evitar medidas intensas de reparación a las víctimas que lucharon contra el fascismo que lucharon contra el fascismo me parece

gracias presidenta buenos días lehendakari sailburuok representantes de asociaciones y plataformas memorialistas

bien efectivamente y como recordarán el pasado diecisiete de octubre

de un mes y medio tuvimos en esta cámara un debate resultado del cual se constató la apuesta mayoritaria de este parlamento por la tramitación de una ley integral de memoria histórica y democrática vasca una ley que dentro de los parámetros del ordenamiento jurídico y del marco competencial vigente lo que pretende es consolidar y dar seguridad jurídica a todo el importante trabajo

años y cuyo objetivo es regular todas las políticas públicas al amparo de los

con el fin de promover la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de quienes padecieron persecución

por razones políticas ideológicas o de creencia religiosa durante la guerra civil y la dictadura y también pretende el fomento de los valores y principios democráticos facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos

no quiero dejar de señalar todo el trabajo realizado hasta ahora por cierto en estrecha colaboración entre las instituciones vascas las asociaciones memorialistas

civil y el franquismo y todo ello con el añadido de la especial sensibilidad social de la ciudadanía vasca y el consenso político existente en esta cuestión

el mayor consenso un consenso que no solamente es posible sino que debe ser posible para tener una buena ley y también para evitar

señorías solo a través de un instrumento que integre todas las políticas y derechos que se requieren en materia de memoria histórica se puede dar satisfacción al derecho a conocer la verdad se puede dar satisfacción a la búsqueda y el esclarecimiento de los hechos de violencia

que padecieron muchas vascas y muchos vascos y también así solamente se puede satisfacer el derecho a la reparación plena y efectiva del daño sufrido y estoy segura que todas y todos en este fuero compartimos que no partimos de la nada que no partimos de cero y esto conviene recordarlo lo ha hecho también el señor arzuaga porque es

el gobierno vasco las diputaciones forales los ayuntamientos la sociedad civil organizada y los familiares de las víctimas de la guerra civil y el franquismo todos en comandita

actuaciones en este campo en los últimos años por ello y de esta manera el proyecto tiene en cuenta tanto el marco normativo estatal

mes y medio con la ley del gobierno socialista de españa del año dos mil siete así como las actuaciones para su desarrollo y la propia normativa aprobada en esta cámara que dio el lugar con el máximo consenso también a la creación

al objeto de desplegar un marco legislativo integral por tanto repito insisto es de justicia recordar la experiencia de las instituciones vascas protagonistas de diferentes y múltiples iniciativas de políticas públicas de memoria el texto

todas las aportaciones de las asociaciones y plataformas

no pueden presentar enmiendas pero todas esas aportaciones se están teniendo en cuenta para el texto que se va a traer a este parlamento y el trabajo de los grupos parlamentarios nuestro trabajo señorías es consensuar el mejor

en sede de tramitación parlamentaria donde puede modificarse el texto original y por lo tanto incluir vía enmiendas cuales quiera posiciones que la mayoría necesaria de modo señor arzuaga que yo le sugeriría que no sustraiga

la labor de este parlamento en cualquier caso siempre hemos dicho y compartimos mayoritariamente que es necesario culminar todo lo que suponga

esto para el reconocimiento la reparación el derecho a la verdad a la memoria y a la justicia de todas aquellas personas asesinadas esclavizadas perseguidas de manos de la dictadura franquista

infame de las cunetas hoy insisto otra vez las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista saben tienen constancia que tendremos una ley

una ley vasca integral que complemente a la estatal desde la convicción de todos de que se la debemos

y la democracia y dicho esto porque hay que decirlo

en esta ley falta algo que no se establecen medidas de recuperación de reparación económica y eso no es cierto porque él mismo ha señalado la ley concretamente el artículo doce y la remisión a la disposición adicional primera de dicha ley se prevé las medidas de reparación de carácter económico encargando este informe para analizar el conjunto de todas aquellas medidas de reparación de carácter económico reconocidas tanto en la normativa estatal que ha señalado

para valorar la pertinencia y viabilidad de indemnizaciones complementarias y proceder en su caso a su propuesta e implementación no parece razonable

que condicionar un debate legislativo en tramitación de la ley con una cuestión que está prevista en la propia ley habrá que ver si modificamos en el trámite

el necesario consenso del que hablaba antes y que hay que decir y yo creo que eso lo compartimos todos que es una de las señas de identidad de todas las políticas de memoria en nuestro país estamos hablando de una ley integral y el informe del que nos habla el señor

de cuestiones nucleares aparte del resarcimiento económico singularmente estoy hablando de atención a víctimas de memoria de dignidad

impulsado iniciativas de recuperación de lugares simbólicos exhumaciones de restos reordenación de archivos investigación y divulgación de hechos históricos elaboración de bases de datos recogida de testimonios

actos de reconocimiento todos nosotros en este parlamento conocemos la diferente normativa de desarrollo de la memoria histórica y no voy a hacer más mención que hay que incluir en este caso y en relación con la reparación económica quiero señalar singularmente el decreto ciento siete barra dos mil doce al que ha hecho referencia el señor

preveía indemnizaciones importantes y finalmente quiero recordar también este consenso al que

que configuró el sujeto institucional y las competencias para el desarrollo de las políticas de memoria esta ley ahora definirá el qué y el cómo hoy la ley

que es en definitiva lo importante de este debate pretende profundizar en un trabajo que ya ha sido realizado y que pretende promover y ampliar las actuaciones desarrolladas hasta el momento dotándolas de una unidad de sentido por todo esto nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad en la que

a este parlamento y además nos ponemos también deberes importantes a nosotros mismos que es agilizar

con la mayor celeridad posible su tramitación porque insisto es necesaria una ley que otorgue una unidad de sentido a todas nuestras políticas públicas en materia de memoria histórica y democrática y que contribuya sin duda a reforzar su seguridad jurídica los estados democráticos no digo

que saldar con quienes fueron víctimas de violencia y represión por su compromiso con la libertad y quiero señalar también qué es lo que se expresa

nuestra memoria democrática desde el pasado y el más riguroso conocimiento histórico que es el modo más firme

la intolerancia y la exclusión para asegurar nuestro futuro de convivencia democrática y de respeto a los derechos humanos

que no compartimos esta forma de actuar y no la compartimos porque lo que consideramos es que con esto se pretende condicionar condicionar el futuro debate legislativo

está en el borrador del que ha hablado usted antes y se debatirá en su momento porque cada cosa se debate a su debido tiempo entendemos que tenemos que hacer

en el trámite parlamentario más allá de todo esto que con esto lo que se pretende es convertir el debate sobre una ley en su conjunto una ley muy importante en un debate concreto sobre un informe concreto de valoración

mucho más que eso las víctimas merecen una ley integral

de muchas más cosas miren he comenzado mi intervención hablando de la importancia que tiene este tema para nosotros y es por la relevancia

queremos una ley completa una buena ley una ley que proteja y dé garantías de verdad a las víctimas y además creemos que es una ley que tenemos que trabajar entre todas y todos y cuando digo todas y todos me refiero a los grupos de esta cámara sí pero me refiero también al gobierno vasco me refiero también a las víctimas a las asociaciones y a las familias de las víctimas y también me refiero a la sociedad civil y nos consta

que así se está trabajando nos consta que la interlocución entre el gobierno y las víctimas

nos consta que se están recibiendo aportaciones para tener un texto lo más rico posible y nos consta que el plazo para hacer alegaciones

hobetzeko prest miren señoras y señores no estamos aquí no estamos aquí para hablar de casos particulares pero me van a permitir que haga una excepción

eso sí tengo una virtud soy del pnv

de ajuriaguerra y sí también soy del pnv del lehendakari iñigo

homenajea a las víctimas del franquismo a aquellos gudaris que en el treinta y seis defendieron la libertad y la democracia y aquellos gudaris

y que muchos de ellos lo tuvieron que pagar incluso con su propia vida

y también estoy muy orgulloso de todas las generaciones posteriores que año a año las han homenajeado en cambio usted señor arzuaga si no me equivoco pertenece a sortu sortu de arkaitz rodriguez

que comparó a los gudaris que en el treinta y seis defendieron la libertad y la democracia

años durante décadas la cercenaron en nuestro país en euskadi

el líder de su partido comparó a quienes defendieron la democracia y la libertad

que es muy difícil que hagamos el camino juntos comprenderá que es muy difícil que lleguemos a un acuerdo

nosotros queremos un acuerdo eso sí usted entenderá que si eso es muy difícil hay algo que es imposible

sobre defensa de las víctimas y respeto a los derechos humanos eskerrik asko eskerrik asko díez jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeak

gracias presidenta lehendakari consejeros consejeras señorías buenos días bien seré muy breve

cuestiones ya se han puesto sobre la mesa en este momento hay una tramitación parlamentaria está en trámite un borrador un anteproyecto de ley sobre memoria histórica donde nosotros entendemos tendrá perfecta cabida

complementaria como la que aquí se plantea en este debate no es una cuestión que va desde luego que tiene que ir en lo que es el trámite del proyecto de ley cuando llegue a la cámara y con normalidad pues cada grupo presentará sus

conocemos también el borrador del proyecto ley

sometiendo se ha sometido ya a exposición pública y alegaciones también conoceremos desde luego se lo pediremos al gobierno cuando traiga el proyecto de ley esas

en el mismo y esas aportaciones que algunas supongo que el gobierno las incluirá en el proyecto de ley otras igual

tendremos también la facultad de incluirlas o de tenerlas en cuenta

es posible y eso que todas esas cuestiones se hayan podido abordar también en un trámite de la misma manera que

lo haya podido plantear también dentro del contexto del debate del anteproyecto de ley del borrador que ya conocemos y en ese sentido pues bueno pues esperaremos desde luego

los grupos que apoyan al gobierno se comprometen a exigir al gobierno celeridad también

de que bueno de que van a ser rápidos en el trámite parlamentario ya lo veremos ya lo veremos por dónde van

por dónde van los trámites en esta casa no será porque lo diga una proposición una enmienda a una proposición no de ley veremos cómo funcionamos

es decir tendrá su debate en este parlamento y será ese el momento de las enmiendas y de las propuestas por eso entendemos que

esta iniciativa que trata de buscar un protagonismo dentro de ese debate no el protagonismo

tenido éxito con determinadas iniciativas y determinadas propuestas en esta cámara determinadas iniciativas y propuestas que hemos

de un rigor clamoroso en la presentación de las mismas en esta cámara hoy

de un proyecto de ley también como todo proyecto ley el mismo

dictámenes de sus informes correspondientes es posible que ahí de sus cuantificaciones económicas

y de medidas de acompañamiento veremos a ver y las estudiaremos y las analizaremos también

ninguna medida complementaria en este momento y por eso no votaremos

nosotros cuando oímos algunas intervenciones parece que queda casi todo por hacer que queda casi todo por hacer y se ha hecho mucho se ha hecho

en relación con las víctimas de la guerra civil las víctimas del franquismo de la dictadura se han hecho muchas cosas da la sensación de que a veces

tenemos muchos temas pendientes y no es así habrá cuestiones por supuesto que sí habrá cuestiones pendientes y se podrán

el sentido y desde luego la propuesta de la iniciativa de bildu parece que no le vale nada a alguno que

gogora no le vale nosotros no somos los más entusiastas con la función con la creación

por la ley que se aprobó en este parlamento por la ley de creación alguna función puede desplegar en todo este sentido no pues bueno no vamos a minusvalorar esfuerzos

anunciado un proyecto de ley que está anunciado y sabemos que está en marcha porque

hay un instituto gogora que también por ley se ha creado este parlamento lo ha creo para hablar de cosas entre otras como la que hoy nos trae a

que no va a ninguna parte y desde luego votaremos en contra de la misma eskerrik asko

cada cosa tiene su momento es cierto el problema es que no estamos de acuerdo en cuál es el momento de la cuestión que debatimos hoy y la cuestión que debatimos hoy que trae el señor arzuaga

es muy concreta nuestra coalición nuestro grupo parlamentario va a votar a favor

proposición no de ley porque pensamos precisamente que el momento es antes de que se apruebe

es decir nosotros compartimos que en esa ley se tiene que incluir la cuestión de la reparación económica

en esta cámara al respecto de la ley de memoria histórica este ha sido

de discusión y por lo tanto es uno de los asuntos que cuando tramitemos la ley en esta cámara tendremos que dirimir y marcar posición los diferentes grupos y llegar a acuerdos y por lo tanto si se necesita un informe

tampoco nos parece una condición indispensable que haya una comisión que haga ese informe porque puesto que es gogora quien ha elaborado ese borrador

ocupado de esta cuestión pero gogora no lo ha hecho gogora no lo ha hecho y por lo tanto nos parece bien que se pida al gobierno

que hagan ese informe porque precisamente con ese informe tendremos mucha mayor facilidad en el debate

en la ley por una cuestión muy importante una de las cosas por las que nuestro grupo ha defendido que hace falta una ley de memoria histórica es porque las políticas de memoria histórica en el caso de nuestra comunidad autónoma al margen de que se haya hecho más o menos están

del gobierno y del instituto gogora y esa es una de las principales carencias que nosotros encontramos en las políticas de memoria histórica en nuestra comunidad y por eso hemos defendido que debería haber una ley de memoria histórica para nosotros no tiene ningún sentido

que los grupos que apoyan al gobierno parece que también consideran que tiene que haber una comisión de expertos que haga ese informe para nosotros no tiene ningún sentido que esa comisión sea mandatada a elaborar el informe durante el primer año después de la aprobación

el informe tiene que ser previo al debate que tengamos que tener en este parlamento sobre esa ley y nosotros desde luego no podemos entender yo creo que iría un poco más allá

pero no he escuchado ninguna argumentación seria contundente para explicarnos ustedes creen que ese informe se debe hacer después de aprobada la ley he oído muchas cosas he escuchado cómo algunos

pero no he escuchado un argumento serio nuestro argumento para respaldar la iniciativa

y es claro vamos a debatir una ley de memoria histórica en este parlamento y nosotros queremos debatirla en la mejor de las condiciones

hay discrepancia sobre cómo se tiene que abordar la cuestión de la reparación económica de las víctimas de la dictadura del golpe de estado fascista y por lo tanto si todos o la mayoría estamos de acuerdo en que tiene que haber un informe tiene que ser previo al debate es la única manera de que ese informe sea útil

por la que no se quiere que ese informe sea previo al debate y es que efectivamente la ley sea laxa y permita

se pueda seguir haciendo política de manera discrecional con esta cuestión

y yo no voy a hablar del conjunto de la ley de memoria histórica porque creo que hoy el debate no era tanto la ley de memoria histórica hoy el debate era una cuestión muy concreta esa ley

de la reparación económica y por lo tanto esa cuestión concreta en la iniciativa que nos presentan marca claramente

en la ley y para nosotros esto es muy importante es más ni siquiera comparto un elemento de la iniciativa del señor arzuaga el elemento temporal donde

de seis meses al gobierno lo cual eso nos llevaría al mes de junio y por lo tanto en nuestra opinión

como nos están diciendo hoy los grupos que apoyan al gobierno viene con tiempo también es verdad que me parecía absurdo hacer una enmienda a la totalidad modificando simplemente

me gustaría aprovechar también para decir una cosa para nuestra coalición la cuestión de la reparación económica de las víctimas no es ni de lejos el asunto más importante que debe abordar esa ley es cierto no es el asunto más importante

de memoria democrática de este país pero es un asunto que no se puede evitar que no debemos evitar y que debemos también cumplimentar es un asunto importante y no se trata de contraponer como me ha parecido entender

no se puede contraponer unas cosas con las otras y eso me ha parecido entender y hoy la iniciativa que se traía era sobre este asunto muy muy concreto y desde luego no se trata de sacar

en un partido plagado de muertos de torturados y de víctimas de la dictadura y de mujeres y hombres que lo dieron todo por la libertad de euskadi por la defensa de la democracia de la segunda república pero no estábamos hablando

de lo que cada uno tenemos en nuestra mochila partidaria y por lo tanto a mí me parece que

embarrar un debate como este con otras cuestiones a mí también me molesta cuando sortu compara algunos militantes de eta de los años ochenta

y qué y qué qué tiene que ver eso

es una buena iniciativa a mí me parece que eso sí que es una falta de respeto

vamos a abordar una ley de memoria histórica ese grupo como el resto de grupos está aquí porque les han votado por decisión popular

y trae una iniciativa y yo me canso mucho y no soy precisamente amigo de muchas de las tesis de sortu

se utilicen estas cuestiones para embarrar y se lo había escuchado muchas veces al partido popular hoy el señor barrio no lo ha hecho y lamento mucho de una manera más suave lamento mucho que el portavoz del pnv sí lo haya hecho

si en esa ley se va a abordar y creo que la señora gallástegui

o de sus palabras deduzco que a ellos no les parece mal que en esa ley se aborde de manera concreta la cuestión de la reparación económica de las víctimas

si tiene que haber un informe para conocer con exactitud lo que se ha hecho hasta ahora legislativamente en nuestra comunidad o en el conjunto del estado que nos afecte y qué es lo que queda por hacer y las capacidades económicas para hacerlo

hace falta ahora antes del debate de la ley hace falta ahora si se hace después del debate de la ley

y quedará a discreción de quien lo tenga que hacer en este caso el instituto gogora con que nosotros no tenemos ningún problema

deben quedar bien recogidas en la ley nada más eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

ezta ere gutxiago señora gallástegui una mención

no fue para verificar la necesidad o la adhesión al proyecto de ley que nos trae el gobierno fue para rechazar fue para retirar la ilp que nos trajo la

porque pensábamos que era un texto válido sobre el que hacer el debate porque era un texto ambicioso y porque traía un montón de medidas

me sorprende que usted apele a las alegaciones que pueden hacer las asociaciones etcétera y el montón de información que vamos a tener junto con el proyecto de ley

y utilice ese argumento para negarnos un informe un informe que podía estar

hernández antes de terminar esta legislatura

los debates y podemos tener algo sobre debatir todos conjuntamente y hace una interpelación al artículo doce donde no prevé ni una sola medida ni una sola política pública de reparación ni una sola lo único que dice es

esas son todas las medidas de reparación que nos trae la ley y a las que usted opta

que traerá un informe miren ustedes ahora parece que les entra prisa pero tampoco mucha con la enmienda que han traído

tal vez ahorrar algún mes acelerando la tramitación del proyecto no sé si

anden más rápido tal vez pidiendo a las asociaciones memorialistas y de víctimas que no

o nos piden al parlamento que nos demos prisa no sé si no presentando enmiendas les entra prisa pero poca les digo porque hay algunas

y les voy a decir que además no tienen mucha prisa y esto va referido al pnv porque en el dos mil ocho

eta ezker abertzalea y han pasado once años y aquella comisión de la verdad que se solicitaba

no está por ninguna parte y dice el señor díez que el gobierno

once años dónde está la comisión de la verdad que ustedes apoyaron con aquella

y ahora quieren ahorrar tal vez un par de meses yo quería ahorrar algo de tiempo efectivamente teniendo ese informe y pudiéndolo valorar mire imagínate imagínense ustedes que esa

expertos valoren la posibilidad tal vez analicen las medidas de reparación las medidas de indemnización o resarcimiento imagínense que se hubiese puesto esa iniciativa ese artículo en otra ley para reparar a otras víctimas por ejemplo a la ley de víctimas del terrorismo que tiene

de medidas de reparación imagínense menudo escándalo que se montaría porque yo creo en la igualdad de trato entre las distintas víctimas y si veo los baremos

que trae una ley u otra a unas víctimas u otras me encuentro con que a una víctima de eta se le indemniza con doscientos cincuenta mil euros a una víctima del estado vale la mitad

euros y una víctima del franquismo en su cuneta vale cero

cero euros parece que conocer medidas

no dar este debate es lo que condiciona el acuerdo

no sé con quién querrán sacar esta ley señor díez pero con estas bases y hurtando el debate con eh bildu difícilmente con la arrancada de

afortunadamente la ciencia avanza que es una barbaridad y

porque esto es como la prueba diabólica probar lo que uno no ha dicho al final todo consta en acta y ahí

lo que se ha manifestado por parte de la representante del grupo socialista en este caso yo en relación a la apelación a las asociaciones para

informe en los plazos en los que plantea expresamente bildu

insisto es que el artículo doce de la ley reconoce expresamente las medidas de reparación económicas las remite a la disposición adicional primera de dicha ley de la misma manera que también se remiten a otras cuestiones que son muy nucleares y muy importantes como ha dicho el señor

la reparación económica no es lo más importante ni siquiera

de esa remisión que se hace a otra serie de políticas muy o acciones muy importantes de memoria histórica que pasan a

pero cada uno plantea lo que crea oportuno plantear en cualquier caso yo insisto en lo que ya he insistido más de una vez

unos tiempos convulsos y en los que se está pretendiendo liquidar la memoria histórica todo esto que hemos conseguido hasta hoy

que todo ese contacto ese consenso ese máximo consenso que ha sido como he dicho antes una de las señas de identidad de las políticas públicas de memoria en euskadi quede

que hay determinados grupos de este parlamento que no están

comprometidos con esto qué es esto de que esto es una ley laxa

que esto es una ley que pretende dar una unidad de sentido a todas las políticas de memoria histórica y por eso porque ya ha habido muchas políticas de memoria histórica se hace

y se remiten a posterior desarrollo o una serie de medidas incluidas las de reparación económica incluidas

víctimas del franquismo por cierto ya han tenido por otras vías con todos esos decretos a los que ha hecho usted mención desde hace más de dos décadas en euskadi

cuál es la razón por la que tiene que ser simplemente una cuestión que va a dar un escollo a un consenso simplemente cuál es la razón por la que tiene que ser un año o en el plazo de seis meses desde ahora por qué por qué

si está recogido aquí esto es simplemente para hacer una cuestión vamos a hacer de esto

este informe esté antes de lo que ustedes plantean o no porque las cosas tienen que hacerse con criterio y con seguridad

jurídica como de análisis eso es lo que se está pidiendo señorías absolutamente nada más en cualquier caso insisto en lo nuclear vamos a dejar

que este parlamento parezca que deja constancia

tenemos una ley que va a ser una ley pionera pionera no pero va a recoger todo lo que hemos hecho nosotros de manera pionera durante todos estos años démosle paso a la tramitación y hagamos de esto otra vez la punta de lanza de las políticas de memoria en euskadi con una ley integral que va a satisfacer las necesidades de todo el mundo en todos los aspectos no solamente en la reparación económica

no es ni de lejos lo más importante gracias

que hemos hurtado el debate no precisamente lo que hemos hecho ha sido evitar

darle la relevancia que merece a este tema y creemos que tiene que ser debatido en un debate en una ley integral

consideramos que una ley tiene mayor importancia y ha preguntado

es en la propuesta de ley que ustedes trajeron a esta cámara cuánto valía una víctima valía lo mismo que una víctima de eta en cuánto lo valoraron porque hablan de lo que valora el texto del gobierno en cuánto lo valoraron ustedes era el mismo valor que una víctima de eta

no sé qué comisión de no sé qué órgano pues es el consejo rector de gogora del que usted es miembro señor hernández a pesar de su intervención

hacia nosotros siento decirle que es que estamos de acuerdo en el grueso estamos de acuerdo en que a usted también le molestan las declaraciones de sortu estamos de acuerdo en eso no y estamos de acuerdo también

con otros aspectos de la ley simplemente nosotros lo que entendemos es lo que le decía al señor arzuaga que preferimos que el debate sea dentro

y hilando con eso usted nos dice que ha faltado argumentación yo considero que no ha faltado argumentación precisamente nuestra argumentación es esa

tan importante como este y finalmente parece que no ha sentado bien el tono con el que me he dirigido al proponente

a veces nos molestan las lecciones de quien menos las pueden dar yo reconozco que en su partido hay muchísimas víctimas y por lo tanto a usted le reconozco una autoridad moral una legitimidad

para ir dando lecciones por ahí y a veces algunos nos cansamos de que quienes no tienen nada que decirnos
sean los que van dando lecciones a los demás eskerrik asko eskerrik asko díez jauna barrio jaunak

yo creo que no hace falta autoridad moral para debatir si nos parece oportuno

antes del debate de la ley o posteriormente a que la ley se debata para eso no hace falta autoridad moral yo no vengo a los debates de memoria histórica

con una especial moral porque milite en determinado partido no no vengo otra cosa es que bueno se utilicen ejemplos

y yo lo que digo lo pienso señora gallástegui es verdad que a veces no digo todo lo que pienso porque creo que hay que ser prudente también en esta vida pero tenga usted la seguridad de que yo todo lo que diga en esta tribuna es porque lo pienso

y si yo he dicho que para nuestra coalición la reparación económica no es la cuestión más importante en las políticas de memoria democrática es porque así lo pensamos pero he dicho que también he dicho también

es una cuestión importante que debemos abordar y que creemos que debemos abordar en la ley y que creemos que debe estar bien recogida en la ley y esa es la cuestión importante si el informe se hace a posteriori de aprobarse la ley lo más probable

es que la ley no recoja la cuestión de la reparación económica o la recoja en los términos que está ahora el borrador que en nuestra opinión en nuestra opinión

que haya una discreción a la hora de luego aplicar cómo tienen que ser esas reparaciones económicas y es verdad si en otras leyes diferentes pero que tratan cuestiones de diferentes víctimas se recogen indemnizaciones

nosotros creemos que se debe recoger y por eso apoyamos esta iniciativa

es que ese informe se haga para que abordemos el debate de la ley y nosotros pensamos que es absolutamente necesario que si hay un informe lo tengamos antes del debate de esa ley si no esa ley si no esa ley pues no tendrá recogida esta cuestión y nosotros desde luego nosotros ya sé que no se ha dirigido a nosotros en esta cuestión pero nosotros no estamos prejuzgando el final de cómo va a ser esa ley de memoria histórica

y no sabe nadie en esta cámara tampoco los miembros de mi grupo la posición que va a tener

respecto al resultado de esa ley porque tendremos que esperar a los debates y a ver cuál es el resultado y no vamos a utilizar este tipo de debates o este tipo de iniciativas para prejuzgar o precuestionar futuribles y por eso yo me he centrado mucho en la cuestión concreta

porque la cuestión era muy concreta se pedía que se encargase a un grupo de expertos un informe para analizar la cuestión

económica de las víctimas de la dictadura eso es lo que pide la iniciativa y a nosotros si nos parece que esto es oportuno

nos centramos en defender esta cuestión y claro que vamos a ver en el debate a mí me cuesta entender la posición del grupo socialista porque no he acabado de entenderla

esté en esa ley de memoria histórica y esté bien recogida pero hoy la enmienda que presentan ustedes de la mano del partido nacionalista vasco

nos indica que las intenciones son que no esté recogida y ojalá nos equivocásemos pero eso es lo que nos indica y nos preocupa nos preocupa

que llevamos con esta cuestión para nosotros es preocupante porque ahora todos hablamos de la ley de memoria histórica y ahora todo el mundo trabaja mucho y el gobierno trabaja mucho

y no es para reprocharlo que la memoria histórica ya no la ley la memoria histórica no estaba ni en el calendario legislativo de este gobierno

y se ha retrasado mucho tiempo y seguimos viendo cómo ponen ustedes trabas hoy a una cosa que nos parece absolutamente elemental

porque gogora tendría capacidad perfectamente para analizar

hasta este momento y hacer una propuesta pero no la ha hecho y por eso entiendo no quiero interpretar las intenciones del proponente pero por eso entiendo que el señor arzuaga presenta esta iniciativa y por eso creo que la tenemos

porque para ese debate necesitamos ese informe si todos coincidimos en que hace falta ese informe lo necesitamos para ese debate para abordar la ley y eso no es

de una herramienta más para abordar ese debate con rigor para abordar ese debate con rigor y para no vender humo a las víctimas

acabo ya señora presidenta y por eso si hace falta un informe hace falta para el momento del debate y el momento

sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi muskiz tres de marzo de dos mil diecinueve de este año un incendio

quemándose y en los vídeos que cuelgan los vecinos en las redes se escucha lo acaba de prender

detrás de este video detrás de este incendio intencionado un albergue provisional en el polideportivo para acoger a los vecinos desalojados una autovía cortada junto a la refinería de petróleo más grande de la península ibérica y ciento cincuenta personas trabajando para la extinción efectivamente la ertzaintza investiga este incendio y descubre

incendiario no voy a hablar de este incendio este incendio es un ejemplo de lo que sucede cuando se investiga un incendio ese mismo día

hubo otros cuatro incendios uno en el monte ganguren a las puertas de bilbao otro en amoroto

estos cuatro no se investigaron estos cuatro no se investigaron

disuasio zaintzarekin batera dice el dicho que prevenir mejor que lamentar prevenir mejor que lamentar es un principio básico de la seguridad es un principio básico de prevenir y para ello necesitamos investigar los incendios necesitamos investigarlos para que quienes los provocan

se provocan los incendios esto lo dice la ley estatal de montes elaborar informes de investigación y cuando se detecten indicios de delito

también lo dicen los planes de protección civil del gobierno vasco para elaborar los informes hacen falta brigadas de investigación de incendios forestales y personal con medios y formación adecuada y en euskadi eso a día de hoy no está pasando sí

pero en bizkaia por ejemplo no en bizkaia se confunde la investigación de incendios con una mera recopilación de datos estadísticos acerca de la hora de la extinción

y eso no es un informe de investigación porque ni determina las causas ni el punto de inicio ni por supuesto permite identificar a los culpables

por lo tanto sin un informe de investigación de incendios lo que tenemos en este país es impunidad impunidad ante los incendios y por lo tanto por lo tanto como no hay informes de investigación o no los hay en todos los territorios lo que sucede

con un veintinueve por ciento de superficie forestal en la medida en que investiga sus incendios tiene solamente un veinticinco por ciento de los incendios que suceden euskadi y solamente un dieciocho por ciento de los más graves que son los de más de una hectárea

con una superficie forestal del treinta y dos por ciento es decir

sin embargo tiene el cincuenta por ciento de los incendios y el sesenta y cinco por ciento

si se investiga hay menos incendios si no se investiga hay más incendios son más graves y resultan impunes a estas alturas

si las diputaciones no hacen su trabajo pídanselo ustedes a las diputaciones en las juntas generales el gobierno vasco tiene una competencia en esta materia la competencia en materia de extinción de incendios efectivamente es de las diputaciones forales y son las diputaciones quienes

de incendios forestales pero y aquí viene la competencia del gobierno vasco el departamento de seguridad a través de la ley de gestión de emergencias y a través de lo que indica el plan especial de emergencias por riesgo de incendios forestales en el país vasco dice

la prevención de los incendios y dice además qué medios y recursos se deben poner a disposición en concreto en el capítulo once por lo tanto

del gobierno vasco le corresponde le corresponde verificar que las diputaciones forales tienen todos los medios que dicen tener que dicen tener para afrontar la prevención y la extinción de los incendios forestales

la ley de atención de emergencias dice claramente que es obligación legal de todos los intervinientes que los recursos estén directamente conectados al ciento doce pues bien

eliminó la centralita de emergencias de los agentes forestales que entre otras cosas entre otras cosas supervisada la realización de las ocho mil quemas forestales que se hacen en bizkaia cada año

ahora mismo lo que tenemos es un operario de una empresa privada con un móvil localizable con un móvil en el monte en ese monte donde a veces no

la proposición no de ley que presenta nuestro grupo hoy es que el gobierno vasco se implique se implique en comprobar que las diputaciones tienen los planes que precisan los medios humanos que necesitan y los protocolos de respuesta que necesitan

gracias señora presidenta señores consejeros señorías tomo la palabra en nombre del grupo

que ha presentado el grupo elkarrekin podemos referente a la investigación de los incendios forestales de euskadi que fundamentalmente pide y es por lo que insta al gobierno en su primer punto a poner en marcha brigadas de investigación de incendios forestales dotarlas de medios técnicos y materiales y formación

creo señor becerra que con la comparecencia de los representantes de los guardas forestales en la comisión de medio ambiente el día dos y anteriormente en la comparecencia referente a los delitos medioambientales quedó claro

es necesario en coordinación con el resto de las administraciones competentes crear por ley el cuerpo de agentes forestales como por cierto

creados y con funciones con funciones entre otras como pueden ser la policía la custodia y la vigilancia para el cumplimiento de la normativa legal

flora caza pesca incendios forestales ecosistemas aguas continentales vías pecuarias espacios naturales protegidos geomorfología paisaje

y al medio natural intervenir en los trabajos de prevención y detención y extinción de incendios forestales y como no puede ser de otra manera intervenir en la realización de la investigación de las causas de los incendios

a nuestra normativa los planes como el de emergencias por riesgo de incendios forestales de la comunidad autónoma vasca los protocolos y actuaciones que están en ellos también los planes de las diputaciones forales que tienen los planes de emergencias como le digo es necesario una ley

de agente de la autoridad lo que hoy los guardas forestales carece y su estructura determinará qué unidades especiales establecerán digo por si serán brigadas de investigación de incendios forestales o serán

no tienen por qué ser brigadas de investigación se pueden llamar de otra manera hay comunidades autónomas que las llaman de otra manera por lo tanto esto señor becerra en referencia al primer punto de la proposición no de ley que nos plantea luego

que en el apartado trece por ejemplo habla de cómo implantar y cuál es el mantenimiento del plan los recursos y dice ese plan que se elaborarán informes sobre emergencias ocurridas y el funcionamiento del plan bueno yo nosotros nuestro grupo ha pedido informes que estén elaborados desde el dos mil dieciséis que se aprobó informe hasta el día de hoy

no puedo hablar no lo sé y ese plan también habla de los protocolos que se deben de establecer y esto enlaza con el punto tres donde usted pide

y que también está recogido en una enmienda de transacción que hemos firmado el grupo popular con los grupos del gobierno

punto que se pide ese protocolo para investigación de incendios forestales por lo tanto de alguna manera su iniciativa está recogida también en la enmienda de transacción nosotros en la enmienda que aportamos a esta iniciativa

punto tres de la enmienda de transacción y lo que décimos

reiteradas veces no hacemos referencia a la importancia que tiene el sector forestal

del primer sector sector primario y décimos que tanto gobierno vasco junto con las diputaciones deben poner en marcha medidas para hacer del sector forestal una actividad

de forma sostenible las masas forestales porque esto es una manera de prevenir la buena gestión de las masas forestales y también hablamos de que tiene que convivir con la ganadería extensiva con el fin de conseguir

y el aprovechamiento de la biomasa forestal como recurso renovable local del medio rural esto debería ser así y trabajar todos en esta dirección hablaba usted de guipúzcoa y de las hectáreas de guipúzcoa yo tengo aquí unos datos que son del sábado de una

en el diario vasco y habla que la masa la superficie de guipúzcoa de bosque es un sesenta y tres por ciento

en cien años se ha multiplicado por cuatro esta superficie

qué proporción de crecimiento tenemos en cuanto al aumento de volumen de

la elevada edad de los mismos hace que el abandono sea uno de los principales desafíos de la gestión de los bosques

indirectos en guipúzcoa por lo tanto pues los árboles son el recurso renovable más

pero esto venía paralelo a una entrevista que se le hacía a un propietario de bosque a la vez ingenio de montes no y le preguntaban que cómo ve él el sector y él hablaba de la gestión del bosque

un recurso renovable de kilómetro cero que genera riqueza económica que ofrece servicios de ocio para la ciudadanía

rural un elemento muy importante por el contrario un bosque no gestionado es una oportunidad perdida el bosque abandonado no nos provee de madera es intransitable se el riesgo de incendio se disminuye los balances de captura de ce o dos y no genera riqueza económica y le decía qué riesgos le preguntaban qué riesgos se han de afrontar y cómo cree que debería de hacerse y decía

las plagas las enfermedades las inclemencias climáticas los incendios ponen en riesgo su integridad

y el deterioro del estado sanitario de los árboles y luego le preguntaban por el futuro

ambientales al territorio también con unos propietarios forestales jóvenes y con una ciudadanía que valore nuestro trabajo y que a su vez disfrute de los bosques

pedimos a la sociedad y a la administración que nos acompañe en este camino con el compromiso

nuestros bosques bueno yo creo que

y creo que en eso tenemos que colaborar todos y como le decía su iniciativa creo que el punto primero no está recogido pero porque para ello necesitamos una ley que dote a los agentes

forestales que les dé autoridad y que luego

desarrollen las brigadas especiales o los equipos especiales de atención para determinadas circunstancias como puede ser la investigación de los incendios

presidenta señorías la iniciativa que presenta el señor becerra afirma que la investigación de incendios forestales es insuficiente lo ha reiterado aquí y propone que se pongan en marcha brigadas de investigación de incendios que

de prevención y defensa contra los incendios forestales y que se realicen protocolos de actuación ante infracciones y delitos medioambientales entre diputaciones gobierno y fiscalía a este respecto quiero señalar que la ley de territorios históricos ya establece de quiénes son las competencias en la investigación de incendios forestales

a través de sus guardas forestales medioambientales y bomberos y para la investigación antiincendios constitutivos de delito

de la policía científica por lo tanto no corresponde al parlamento la tutela de las diputaciones forales

y también hay que señalar que la academia vasca de policía y emergencias ya da la formación necesaria

además hay que recordar que todos los municipios que por ley están obligados a tener planes de emergencia municipales

lo tienen esto afecta al noventa y cinco por ciento de la población de la comunidad autónoma vasca la comisión de protección civil a su vez conoce los planes que elaboran las diferentes instituciones porque en las diputaciones forales no se elaboran y los presentan

y el conjunto de planes cubre la previsión de planificación respecto a protocolos de coordinación la disposición institucional es favorable y siempre está abierta a la mejora que sea necesaria dicho esto

estos días se ha llegado a una enmienda transaccional en la que se plantea lo siguiente insistimos en velar por mantener actualizado el plan especial de emergencias de riesgos de incendios forestales insistimos en la continuidad de la colaboración con las diputaciones forales insistimos

y la fiscalía insistimos en la importancia

una actividad estratégica dinamizadora del medio rural que gestione de forma sostenible

revalorizando los productos forestales y el aprovechamiento de la biomasa forestal y digo insistimos porque

hemos hecho distintas iniciativas y se ha suscitado este debate en repetidas ocasiones en este parlamento pero si se plantea reiterarlo

porque efectivamente sobre lo que se propone ya se está trabajando y se seguirá trabajando muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

legebiltzarkideok menos mal que no hay mucha expectación con este debate porque así menos gente va a poder escuchar esta lamentable voz que mi edad y la gripe me están trasladando sé que en estos momentos nos ocupan cosas muy serias

de este gobierno lo que no debería quitar que

en minutos de la basura y no me lo tomen con la semántica estricta sino más bien con la nueva concepción de que todo debe ser de reciclar

y desde este parlamento se remite directamente a las instituciones a las que les corresponde que no son otras que las diputaciones forales ya se presentó hace un año una pnl similar en aquel caso el grupo popular terminó por retirarla

ya que está meridianamente claro a qué instituciones les corresponde la materia de incendios forestales tanto por la propia lth como por los decretos

y es que nos encontramos con una de esas proposiciones radicalmente desubicadas pero claro en estos momentos de agonías ideológicas parece que todo vale

no es baladí se trata de hablar de incendios forestales tema de relevancia para nuestros bosques nuestra economía forestal nuestro medio ambiente y para la seguridad de las personas

y lo que es peor con conocimiento previo de la misma porque si bien el estatuto dio competencias exclusivas en montes a la comunidad

lamina todas las competencias de este país inmediatamente con la lth se la reenviaron a las

y los incendios forestales forman parte del corpus jurídico de la competencia de montes

la proposición original de elkarrekin podemos tras reconocer

que estas pongan en marcha brigadas específicas de investigación de incendios forestales como ya lo ha dicho aquí el señor becerra

entiende que no hay lugar a tal solicitud no

porque aparte de que esa decisión no es competencia del gobierno vasco para nada

no somos quiénes en este parlamento para exigir a la diputación la creación de puestos de trabajo concretos

y todos los que aquí estamos tenemos representantes en todas las juntas generales de los territorios de este país

pero eso no debe significar que a los plenos lleguen asuntos competencias de otras administraciones

sus grupos en las juntas generales de araba bizkaia y gipuzkoa

la creación de estos grupos el segundo punto que propone elkarrekin podemos es más de lo mismo

y defensa contra incendios forestales mire para cumplir un mandato de la ley

siglo pasado de emergencias del país vasco ya desde el noventa y ocho existe un plan especial

uno primero ya se hizo en diciembre del noventa y siete la última actualización de dicho plan se informó favorablemente por el pleno de la comisión de protección civil de euskadi

el consejo de gobierno del veintisiete de diciembre del dieciséis lo aprobó y se publicó en el bopv el once de enero del diecisiete es decir o sea antes de ayer

de incendios es materia foral exclusivamente foral otra cosa es que las diputaciones pidan colaboración al gobierno cuando ocurre un incidente

les corresponde en exclusiva y no solo eso a la hora de la extinción real independientemente de ayudas que soliciten a otras administraciones el mando de la misma de la extinción corresponde siempre a un funcionario de montes de la diputación foral correspondiente incluso

de intentar saber la causa del mismo para que en caso de que consideren que ha sido intencionado o fruto de un delito

posible comisión de un delito y ahora vamos por un momento a la enmienda del pp que en principio parecía ante lo que había solicitado elkarrekin podemos

pues se desarrolla una enmienda que en cualquier caso parecía que era de otra pnl que era otro debate no obstante

el propio señor becerra hizo una propuesta de transacción para que nos pudiéramos identificar todos enmendantes y proponentes la verdad es que

aunque desde aquí le reconozco de verdad cariñosamente el esfuerzo que usted ha realizado que nos ha permitido al pp al psoe y a nosotros

pero usted llegó a encontrar un hilo conductor de las diferentes propuestas que he de reconocer que aunque parecía extemporánea a la enmienda del pp resulta que vista desde la perspectiva de que el monte bien gestionado es la mejor manera de prevenir incendios

y se genera economía rural pues tenía una lógica y una razonabilidad evidente y así ampliando las perspectivas de la proposición lo hemos hecho es lo que tiene seguramente el acercamiento de las fechas prenavideñas todos buenos bueno casi todos somos más buenos

y después seguramente tomamos turrón aunque nos salgan unas resoluciones un poco largas me congratulo de la transacción del modo de ver

me hubiera gustado que elkarrekin podemos se hubiera sumado pero bueno no ha podido ser para ir terminando unos datos de investigación en dos mil quince la ertzaintza investigó siete incendios en dos mil dieciséis trece y en dos mil diecisiete hamalau

es decir de entrada se investigan los incendios o sea

independientemente de que cada año puede ocurrir algún incidente euskadi tiene los trabajos bien hechos porque en este país estamos concienciados aunque se diga que no con este tema también puede ser que por los datos que les he aportado de investigación

termino por señalarles la estadística de incendios forestales de los dos últimos años en euskadi año

año dos mil diecisiete ocho coma cinco hectáreas arboladas incendiadas se ve que no somos un país muy dado a los incendios

acontecimientos excepcionales no solo por la climatología

tenemos buenos planes de prevención y extinción que siendo una competencia de las diputaciones forales se coordinan con el departamento de seguridad del gobierno vasco y eso además de suponer una importante colaboración interinstitucional conlleva a que se requiere menor esfuerzo para investigar nos quedamos con la transacción que hemos firmado

tanto en la actualización de planes de emergencia de riesgos como la prevención extinción e investigación de incendios y que conjuntamente promuevan la gestión del bosque para siendo sostenible revalorice el producto forestal y su biomasa

y pedir continuidad al trabajo bien hecho de diputaciones forales y gobierno he intentado

que los siguientes no se lleven los virus que tengo no obstante recomiendo que puedan incendiar estos micrófonos para que queden

recursos forestales ganaderos eta gobernuko kideek

por la investigación de los incendios forestales eta honetara saiatuko naiz pixka bat atxikitzen iniziatiban

de guipúzcoa se ha tenido que abrir paso a codazos ha tenido que imponerse por la fuerza de los hechos y únicamente por el impulso de los propios guardas forestales que lo componen que se creían su trabajo hoy podemos constatar que existe y además que son eficaces han investigado treinta

año pasado de ellos veinte han concluido en procedimientos administrativos mientras que dieciséis han sido remitidos a fiscalía para que se verifique

de autoridad entiendo y con lo cual tendrá más trabajo más dedicación en unas condiciones laborales en las cuales no pueden desatender otros trabajos

parlamento en qué le toca todo este debate pues porque exigíamos que haya una coordinación entre la

de investigación de incendios que hoy podemos constatar también que no es adecuada no hay un reparto funcional de tareas por las que unos realizan unas cosas y otros otras concretamente

investigación de incendios las investigaciones técnicas de por qué y de cómo ha surgido el incendio

la investigación para establecer su posible autoría y las responsabilidades penales que de ella se puedan derivar y detectamos problemas en la unidad de

especialización están todos que son pocos a todo mucho y en la pluralidad de hechos delictivos que han de conocer además desde esta unidad no hay un agente de referencia para

con el que además se pueda establecer una dinámica de trabajo adecuada desde las guarderías forestales o desde las brigadas de investigación de incendios la actitud de la ertzaintza en muchos casos en vez en términos de coordinación funcional en vez de en términos

en una relación de superioridad de subordinación y esto tenemos que constatar que no está funcionando efectivamente y tal y como marcaba la iniciativa del señor becerra el trabajo de la brigada de investigación de incendios tiene una importancia vital en materia de prevención pero también porque detecta datos y establece estadísticas

de incendios de prevención de recursos necesarios para su extinción de iniciativas de prevención etcétera estadística sobre las que por cierto las propias

debería de establecer el debate sobre recursos sobre necesidades y sobre cómo enfrentar mejor la prevención y la eliminación de incendios estábamos de acuerdo con la iniciativa que salía que

trajimos enmienda y veíamos con preocupación en cierta manera que las enmiendas del pp y el pnv

de incendios ahora hay una transacción al respecto tengo que hacer un comentario en el primer punto se habla de mantener actualizado conjuntamente con las diputaciones forales el plan especial de emergencias de riesgos de incendios forestales

ver este plan especial no

no hace ni una sola mención a la investigación de incendios cero nada no aparece

me parece que es redundar en el problema o sea en todo caso debería de incorporarse a este plan un

de incendios creo que en cierta manera lo corrigen con el segundo punto porque sí que se habla de una actuación

entre diputaciones unidad de medio ambiente espero también que las brigadas de investigación de incendios con protocolos específicos

de todas maneras creo que era más exigente lo que nos traía el señor becerra creo que es más exigente lo que aprobamos en este parlamento en aquella del veintiocho de junio de dos mil dieciocho vamos a velar por el cumplimiento de los compromisos que se adoptaron en aquella

y por lo tanto nos abstendremos ante la iniciativa transada por parte del

bueno yo viendo un poco la actitud de los diferentes grupos ante nuestra propuesta

esa forma de pasar de puntillas por el problema es un poco similar a la que se está adoptando en todo el país con el tema de los incendios forestales es decir pasar de puntillas de un problema que existe pero que mientras vivamos en un país relativamente húmedo

sistemas de extinción relativamente viables

en álava murió una persona en un incendio forestal señor tellería

estamos hablando de bienes materiales que los incendios acaban con ellos yo precisamente para mimetizarme un poco en ese debate

regalo navideño señor tellería le regalo intenté mimetizarme y en vez de exigir a las diputaciones que cumplan la ley que cumplan la ley que no lo están haciendo

le puse recomienda a las instituciones vascas ni siquiera a las diputaciones recomienda a las instituciones vascas ni ahí han entrado

pasar de puntillas por el problema no incluso

no quise ni meterme en las interioridades de cómo se funciona en gipuzkoa me limité a mencionar que al menos tienen medios que al menos tienen medios no quise ir más allá porque la

simplemente me he limitado a manifestar que si hay medios para investigar automáticamente hay menos incendios es decir la investigación es un medio

bueno pues los grupos que sustentan al gobierno hablen de proseguir la colaboración porque proseguir la colaboración significa que hay colaboración y no hay colaboración y esa colaboración que se pedía en la

lleva sin cumplirse desde junio de dos mil dieciocho la señora lópez de ocariz ha dicho dos cuestiones que a mí me parecen fundamentales fundamentales

la primera es cómo están nuestros agentes forestales en el país efectivamente necesitaríamos un cuerpo único de agentes forestales no lo tenemos pero tenemos tres uno en cada diputación

privatizados son cuerpos a los que se les han quitado las competencias que la ley les da son cuerpos cuyos informes terminan en el cajón

cuando la ley dice que tendrían que ir directamente a la fiscalía y sin embargo la potestad autoorganizativa de las diputaciones hace que los informes de los agentes forestales acaben en un cajón la segunda cuestión

su aportación dentro de la posible transacción en ella usted hablaba de que la gestión de las masas forestales debe convivir con la ganadería extensiva

según las estadísticas las frías estadísticas el setenta por ciento de los incendios forestales están provocados por ganaderos y ganaderas están provocados por ganaderos y ganaderas y estadísticamente les digo que desde aquí esta fecha noviembre diciembre hasta febrero marzo el setenta por ciento de los incendios de este país van a estar provocados por ganaderos y ganaderas para que durante la primavera crezcan

y esto es así y nadie quiere decir nada y todo el mundo pasa de puntillas sobre el problema yo no sé si mi propuesta señor tellería es de los minutos de la basura o no lo que sí espero es que desde aquí hasta marzo

el hecho de no exigirle al departamento de seguridad que supervise en virtud de sus competencias que las diputaciones hacen todo lo que tienen que hacer en esta materia

tener más o menos hectáreas quemadas pero el día que muera una persona

ya lo hemos visto este verano ya lo hemos visto en otras ocasiones en otros lugares y en otros países aprendamos de lo que les pasa a otros antes de que nos suceda aquí eskerrik asko

nos preocupa este asunto y nos preocupa mucho y por eso llevamos más de un año trabajando en ello y puedo asegurarles que nuestra intención es que en los próximos

metamos la iniciativa de que se traiga una ley aquí pero desde luego

no sé si la vamos a necesitar porque el señor becerra ya ha investigado los incendios ha llegado a la conclusión

la mayoría cuál es la causa le falta encontrar al que dio fuego no la verdad es que creo que

nosotros insistimos en la necesidad de tener unos agentes forestales con plena competencia de autoridad y que eso nos va a reforzar todo el sistema y lo demás son buena fe claro que sí el cuerpo de gipuzkoa pero luego a la hora de hacer una denuncia y detener a una persona o a hacer otras actuaciones es como si la hiciéramos uno cualquiera de nosotros

de presentar una denuncia o ante un hecho por lo tanto de verdad estamos en una situación en eso de déficit no creo que es la hora de presentar en esta cámara que el gobierno elabore un proyecto de ley en estos términos no procede en este momento por lo tanto bueno creo que estamos mirando a la próxima legislatura que aquí tenemos un fallo importante lo reconocemos todos y que efectivamente la buena gestión del monte

que sí el plan de emergencias tiene puntos de prevención y medidas de prevención lo que no sé es si se están ejecutando y de ahí que necesitaremos un informe para que nos

importantes en ese plan pero no sabemos cómo están desconocemos por completo por lo tanto nosotros creemos que en este momento de legislatura lo que procede es evaluar lo que tenemos y afrontar la nueva legislatura con proyectos

eskerrik asko berriro no iba a salir pero bueno

a ver si nos aclaramos las diputaciones y el gobierno son instituciones distintas que a veces en determinadas materias se coordinan no

hay tres diputaciones forales diferentes y hay tres organizaciones de carreteras diferentes pues porque este país está organizado de esa manera y no pasa nada y se coordinan suficientemente y de hecho tienen un plan de prevención de incendios el plan de prevención de incendios es lo importante

es un plan de prevención de incendios eso es lo que hace que existan menos y que sea menos necesario investigar pero inicialmente investigar lo hace el que es el encargado de prevenir directamente el incendio y apagarlo que es la diputación y si encuentra un posible delito

que será un delito de distintas características puede ser ambiental ahí es donde hay una diferencia lo que es la vigilancia ambiental y la vigilancia forestal no necesariamente la vigilancia de incendios tiene que ver con los guardas de materias de delitos ambientales el incendio no es un delito ambiental por sí mismo

puede llegar a serlo pero no lo es y en eso estoy de acuerdo con la señora lópez de ocariz usted ya ha dicho la mayoría de incendios quienes los provocan mire no es así la mayoría de incendios que se ha la mayor reducción de incendios en este país se ha provocado cuando se prohibió

los incendios y a partir de ahí podemos deducir era provocado no eran errores malas gestiones

no era un delito porque quemaban mal era una mala ocupación del incendio porque yo por la misma le puedo decir y ese incendio que usted se ha referido del eucaliptal al lado de petronor

en un montón de gente un eucaliptal los de equo los ecologistas lo han quemado

es que esas conclusiones tan sencillas tan frívolas no se pueden hacer

entonces con cuidado y por último resulta que hay una diputación foral que parece que tiene bien lo de investigación ay casualidad lo tiene bien hecho la de gipuzkoa a pesar de la propia diputación son los currelas

a pesar de que el diputado no quiera y lo hemos hecho miren por ahí no paso por ahí no paso la diputación tiene sus responsables serán los que voten

no se monta una brigada de investigación forestal contra la opinión del diputado correspondiente muchas gracias

señorías buenos días de nuevo bien mi grupo planteó el pasado quince de noviembre una interpelación a la señora consejera de salud en relación con las terapias avanzadas en el sistema nacional de salud en concreto con los medicamentos car

desde aquí desde esta comunidad autónoma saber tratar de conocer cómo se estaban implementando las medidas en relación con esta cuestión

son muchas y abundantes las referencias del periodismo especializado en relación con estas cuestiones de un tiempo a esta parte efectivamente y nosotros planteamos esa iniciativa en primer lugar para conocer lo que estaba trabajando osakidetza en relación con este tipo de terapias avanzadas y también nos llama la atención el hecho de que ningún hospital de nuestra red

estaba formaba parte de los hospitales acreditados por el ministerio para tratar pacientes con terapias car son muchos los hospitales son once

también hay la fé y el universitario de valencia el gregorio marañón el niño jesús de madrid el complejo asistencial de salamanca en castilla león

un hospital dentro de esos acreditados en la interpelación ya se dijo que momento no había sido posible pero que se estaba trabajando en la acreditación del hospital universitario

gracias hospital universitario donostia para esa acreditación y para trabajar con las terapias car con las terapias avanzadas en este caso no y el hospital donostia y biodonostia también como

a esa labor es decir nosotros recordábamos y lo vuelvo a hacer en esta moción que los avances en la medicina de precisión y la adaptación a las características individuales

dentro de esos avances había que destacar

terapias avanzadas que se basan en la recopilación modificación de las células inmunes de los pacientes para tratar su propia su patología

de los pacientes un reto para los sistemas nacionales de salud y en ese sentido también decíamos que el consenso político

en iniciativas constructivas es fundamental precisamente para seguir construyendo de una manera eficiente el desarrollo de esta ciencia y de este avance

en nuestro país entre los medicamentos de terapia celular recordábamos que existe

llamada de forma genérica car cuando se emplean linfocitos t modificados de los pacientes que

el proceso de fabricación puede ser bajo la norma de o bien de fabricación industrial

el proceso de fabricación de las mismas la implantación de estas nuevas terapias requiere un trabajo además interesante

entre diversos servicios de los hospitales para su correcta implantación y el desarrollo de todo el proceso extracción de las células del paciente modificación y transformación en medicamentos de las mismas

que pasa por la adecuada conservación dispensación administración manejo de efectos secundarios y las terapias

hay que considerar en todo momento la importancia de la trazabilidad y la fármaco vigilancia en el proceso

del medicamento recomendó las dos primeras autorizaciones de comercialización

recientemente en dos mil dieciocho el tratamiento ya está disponible en españa contra dos tipos de cánceres la leucemia recordábamos la leucemia linfoblástica

que también recordábamos y sobre esas dos enfermedades con ese tipo de terapias también recordábamos que el ministerio de sanidad

en noviembre de dos mil dieciocho el plan de abordaje de las terapias avanzadas en el sistema nacional de salud y medicamentos car es decir el carácter nacional

en ese sentido se deben potenciar medidas de eficiencia para poder financiar esas nuevas terapias el plan el plan de abordaje de

como objeto organizar de forma planificada equitativa y segura y eficiente la utilización de los medicamentos car y en la actualidad los cart t en el sistema nacional de salud así como la investigación pública y la fabricación propia y pública de esos medicamentos en el ámbito del sistema nacional de salud es decir en unas condiciones que garanticen estándares de calidad de seguridad de eficacia y ese es el elemento fundamental y por eso es importante también tener ese plan como referencia y

a las comunidades autónomas garantizar los mecanismos y potenciar los recursos necesarios

en marcha del mismo requerirá además la adaptación de acuerdos importantes innovadores de gestión

modalidades techo de gasto pago por resultados estrategias

una serie de cuestiones organizativas también importantes y que hay que implementar

la aplicación de las terapias avanzadas es la última esperanza para aquellos pacientes

cabe destacar que en el caso del cáncer infantil entre el ochenta y el noventa por ciento de los niños con la leucemia a la que nos hemos referido

se curan con quimioterapia intensa o trasplantes

pero sin embargo hay muy pocas opciones para los pacientes que no responden a esos tratamientos y ahí está donde se abre un margen de actuación con este tipo de terapias que además en el futuro se complementará y se desarrollará se está avanzando muy rápido también en la implementación de este tipo de terapias avanzadas y tenemos que estar preparados no y ese

un poco más amplia hablábamos de garantizar el centro de referencia parece ser que ya se está trabajando

en que así sea y que sea pronto en relación con esa acreditación del hospital

y con biodonostia también como elemento como factor de investigación importante

hospitales de la red no que se aborden esos procesos a través de la formación y de la implementación de la preparación de los profesionales en relación con esa cuestión queríamos también asegurar

organizativo garantizar las cuestiones terapéuticas en concreto

aunque todo eso no se dice tal cual en la moción sí que hemos entendido que se recoge ese espíritu que nosotros pretendíamos no el espíritu de que fuese una prioridad

de esta cuestión de que tuviesemos esa garantía de que el gobierno vasco

pasando en primer lugar por la acreditación del hospital a partir de ahí se va a poner en marcha todo este tipo de terapias y por eso mismo pues ahí está la moción que hemos firmado todos los grupos parlamentarios

también los no enmendantes pues se sumarán a la misma porque es importante también hablábamos en el texto y lo han hecho en otros parlamentos también de un consenso político que es importante también

a entender que van a ser costosas que van a ser de a veces de cumplimiento de requisitos generales no y en ese sentido

nos movamos en la unanimidad qué decíamos en la enmienda firmada pues que se dé prioridad a las últimas tecnologías y a los tratamientos más innovadores

las terapias de las que estamos hablando y que se sigan promoviendo las medidas necesarias para profundizar

lógicamente lo habíamos hablado aquí todo pasa además por esa acreditación del centro

a favor de la lógicamente del acuerdo alcanzado el plan además

en muchos de los foros de los ámbitos de las comisiones de investigación de tratamiento de organización de todo este tipo de terapia y es bueno que desde luego nuestra comunidad que siempre ha sido pionera siempre ha estado a la cabeza pues no pierda no se retrase en exceso

avance científico médico que desde luego que lo que hace
es salvar vidas muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

nagusia medicina de precisión terapias personalizadas medicamentos car en este caso medicamentos estos últimos dirigidos

estas terapias actúan a través de los linfocitos que una vez

contra el cáncer es una cuestión muy concreta como decía al inicio de mi intervención es un tratamiento que aún se encuentra en una fase muy inicial

tanto a nivel de infraestructuras hospitalarias como de equipos como de recursos humanos bienvenido sea cualquier avance toda investigación dirigida a la curación del cáncer pero no olvidemos como siempre décimos que además de los tratamientos

este caso hay que esforzarse por implantar políticas

de diagnóstico precoz porque esa es sin duda la mejor inversión en salud y podríamos hablar durante horas sobre esto sobre el plan oncológico vigente sobre su grado de cumplimiento sobre las necesidades de los y las pacientes sobre la situación de infraestructuras hospitalarias

profesionales sanitarios que atienden a estos enfermos y enfermas

más convencionales seguro que en torno a todas estas cuestiones podríamos plantear muchas iniciativas y en la mayoría de los casos llegar a acuerdos como ya hemos hecho en más de una ocasión

egiten ari dena por tanto será el hospital universitario donostia junto con biodonostia el centro que participe

es decir el centro está designado como también lo está la red de investigadores e investigadoras que participarán en ese proyecto

donostialdea es por eso que después de conocer la planificación y las intenciones del departamento con respecto a la aplicación de estas terapias

es nuestra labor controlar e impulsar al gobierno mediante nuestras iniciativas pero sinceramente creemos que en este momento no hay impulso

a todos y a todas tal y como ha dicho el señor carmelo barrio y también la señora blanco el pasado pleno de control ya nos planteaba la consejera murga lo que tenía que ver con el plan de abordaje de las terapias avanzadas en el sistema nacional de salud los medicamentos car todos compartimos

ciudadanos y por tanto quedaba claro el compromiso del gobierno vasco qué es lo que se estaba haciendo

por lo tanto no sé si es conveniente o no plantear este tipo de iniciativas como nos decía la señora blanco pero tampoco creo que haga falta utilizar todo el tiempo de intervención en explicar

y qué es todo aquello que hace falta que un gobierno invierta su presupuesto público para que la salud de sus ciudadanos mejore por tanto únicamente el grupo socialista interviene en este pleno

y como digo no creo que haga falta dar una clase magistral sobre lo que supone esto y lo que supone todo aquello que nos explicó la consejera en el pleno de control por lo tanto votaremos a favor como

y seguir trabajando en este pleno y en la comisión de salud en todo aquello que pueda reportar

no siempre hace falta presentar iniciativas parlamentarias en aquello que no hace más que incidir en lo que ya nos planteaba en su día la señora murga nada más muchas gracias

lehendakari jauna sailburuak compañeros y compañeras parlamentarios efectivamente este es un tema complejo es una de las razones por las que no hemos

no es necesario constatar que la mayoría de los parlamentarios y parlamentarias

sobre este complejo tema innovador de las nuevas terapias inmunocelulares del cáncer

que es un poco extraño que lleguen a los parlamentos de todo el mundo también al nuestro pero que hay que abordarlo porque son políticas y además arrastran presupuestos importantes

dicho esto efectivamente no hay ninguna clase magistral que dar sino plantear los

están detrás de la decisión que hemos apoyado y que apoyamos

se incorporen a los procesos de las terapias innovadoras de medicamentos car hasta ahora

la radioterapia y la cirugía no hace más de cinco años que ha entrado

sobre todo en el área inmunocelular como tratamiento una novedad

y es carísimo y no es más que el inicio de la terapia de la principal terapia inmunocelular contra el cáncer

el costo y los protocolos

un tratamiento de la terapia inmunocelular contra el cáncer ligada a los medicamentos

dólares al año esto no es más que el comienzo por lo tanto

la petición que hacemos de que se incorpore a los procesos innovadores de acreditación de centros de acreditación de laboratorios de cogestión de protocolos etcétera es también una invitación al gobierno vasco para que se incorpore a la política de fijación de precios del ministerio

muy complicada puede hacer saltar las cajas de los sistemas públicos de salud en donde el gobierno vasco

no son en el ministerio lo mejor lo más transparente y lo más democrático que conocemos en la toma de decisiones en políticas de salud

estas nuevas terapias y el nuevo plan estratégico

para su financiación recién aprobado lo que invita es a utilizar nuevos métodos de utilización de precios y discutir con las multinacionales farmacéuticas en este caso

discutir sus precios y sobre todo discutir por los resultados

que es un sistema de información que indica los resultados en salud después de la aplicación de estos medicamentos a los pacientes adecuados

hablamos también de participar en el comité de fijación de precios es un problema claro si ves el procedimiento

a ciento veinte grados bajo cero para su congelación y allí se modifican genéticamente y vuelven al hospital de donostia

modificados genéticamente entren en el mismo paciente para que así se pueda organizar bajo el punto de vista celular una destrucción de las penas tumorales efectivamente

no solamente complejo sino que desde que el comité del hospital de car que todavía no tenemos acreditado esperamos que el hospital de donostia sea el próximo

propone un paciente para este tipo de medicación con una leucemia

las dos medidas terapéuticas para estos medicamentos

el ministerio tiene que contestar en siete días en quince veinte días se tiene que hacer la aféresis la aféresis es sacarle sangre al paciente y separar los glóbulos blancos

del resto de la sangre para mandarlo al laboratorio de los de los que han producido el medicamento que son novartis y gilead un mes hasta que llega el medicamento

entre dos y tres meses desde la selección del paciente hasta su trasfusión en nuestra opinión es un proceso complejo todas las consultas que hemos hecho de farmacia hospitalaria

están todos y todas muy atentos a estos procesos tanto del tiempo de duración de tratamiento como de la posibilidad de negociar los precios como la capacidad de los laboratorios de adaptarse a los procesos de negociación

y la segunda reflexión y acabo es que el protocolo que organice el proceso de atención a los pacientes que necesitan sobre todo los infantiles con leucemia que se curan espectacularmente

o con linfoma deben ser determinantes del proceso de atención

recuerdo que hay ocho hospitales acreditados más el hospital negrín de canarias

han producido cincuenta y nueve pacientes desde el ocho de marzo de los cuales se han tratado en todo el estado español veintisiete pacientes y se espera

para hacer un acceso equitativo a los nuevos medicamentos innovadores inmunocelulares para el cáncer entre cien pacientes para leucemia y quinientos ochocientos para linfoma multiplicar por lo tanto

adecuada y racional de los protocolos en la selección de pacientes en la organización de los servicios en los criterios de administración de los medicamentos en la medición de resultados debe ser fundamental no es para el cáncer estos medicamentos es para dos tipos de cáncer no son para todas las leucemias ni todos es para

refractaria que es muy eficaz por lo tanto nos alegramos de que esta moción

lógicas que defiendan la sanidad pública vasca deben ser motivo de pacto en esta cámara siempre lo estamos defendiendo y lo vamos a seguir defendiendo apoyamos esta moción agradecemos a carmelo barrio al compañero barrio su disposición para la discusión agradecemos eskerrik asko kerman la disposición de kerman orbegozo para el intento de consenso

sencilla que es que el gobierno vasco tenga un papel activo en la organización de la

y solamente dos avisos la pasta gansa hay que tener información exhaustiva para tomar decisiones las aplicaciones informáticas que nos den que nos midan los resultados en salud de esta terapia con unos pacientes que nosotros

y la organización de los protocolos ya está los institutos bio ya está el hospital de donostia

lurzorua ekimen horiek aurrera eraman ahal izateko estamos de acuerdo con el espíritu inicial de la propuesta del grupo eh bildu de que hay que promover los nuevos modelos de vivienda porque de alguna manera de alguna manera y en toda manera dan

de vida la dificultad en el acceso de las personas jóvenes se ve en que la edad de emancipación en euskadi es de veintinueve años mientras que la media de europa es de veintiséis la de suecia de diecinueve o la de finlandia de veintiuno

porque del sueldo medio de una persona joven si pide una hipoteca tiene que destinar como mínimo el cincuenta por ciento y si es en alquiler tiene que destinar como mínimo el setenta por ciento pero también da solución a problemas

y hábitos de vida y en este caso de las personas mayores como la soledad los cuidados compartidos o la necesidad de relaciones sociales porque no olvidemos no olvidemos que el setenta por ciento de las llamadas de teleasistencia en este país son por soledad y que en este país hay doscientos cuarenta y cuatro mil personas es decir el veintisiete por ciento de los hogares de los cuales en torno al cuarenta y dos por ciento son mayores de sesenta y cinco años y en torno al setenta por ciento son mujeres por lo tanto los nuevos modelos de vivienda llámense viviendas compartidas llámense cooperativas en cesión de uso llámense viviendas agrupadas o cohabitación

permiten dar respuesta a estos problemas nuevos que tenemos y además

por un lado evitan la especulación con la vivienda y por otro lado moderan el uso insostenible

escasos como son el suelo y la vivienda porque permiten compartirlos que es un modelo muy sostenible que tenemos que ir adoptando

adiskidetasuna bultzatuz hau da emantzipazioaren prozesu integrala en este debate que ya lo hemos tenido en comisión el gobierno

en la ley de vivienda de dos mil quince y así ha venido a decir que no se pueden considerar ni alojamientos dotacionales porque son necesidades no permanentes de vivienda y por lo tanto a las personas mayores no se le pueden aplicar ni tampoco se le pueden aplicar

porque algunos de los integrantes de las iniciativas de promoción de las viviendas compartidas no cumplen los requisitos de no tener vivienda o de tener un límite de ingresos sin embargo sin embargo la propia ley de vivienda y sobre todo el plan director de vivienda dos mil dieciocho dos mil veinte sí incluye estos modelos dentro de sus prescripciones y así el plan director en su línea

incluye las experiencias de vpo en cesión de uso en su acción quinientos catorce iniciativas de convivencia

por lo tanto tenemos que buscar el encaje jurídico para que la ley de vivienda

dé encaje a algo que el propio plan director de vivienda sí contempla como necesario eta ulertzen dugu ulertzen dugu udal esparrua dela egokiena ekimen hauek

la intención y el compromiso para acordar con el gobierno medidas de financiación que permitan la puesta en marcha de estas iniciativas eskerrik asko eskerrik asko

y tenemos problemas detectados que además compartimos entre los diferentes grupos que estamos representados en esta cámara y tenemos dos colectivos concretos que tienen especial dificultad para acceder a una vivienda por un lado son los jóvenes y por otro lado es

mayor eso nos tiene que obligar a buscar herramientas alternativas que muchas veces intenten buscar también otros caminos que no sean

en choque con el mercado que probablemente nos pudiera alargar nos pudiera prolongar ese camino en la obtención del objetivo que queremos conseguir tenemos que poner en marcha nuevos modelos nuevas alternativas nuevas maneras nuevas políticas

para poder emanciparse euskadi tiene un problema los jóvenes vascos tienen serias dificultades

no hay alternativas habitacionales no hay un precio que sea asequible y que permita a esos jóvenes tener una independencia una libertad para poder emanciparse y tener unas condiciones de vida dignas con el sueldo con las condiciones laborales que tienen y en la vertiente de la vivienda es lógico que desde el gobierno impulsar políticas de alquiler y se intenten impulsar y se intente colaborar con aquellas iniciativas que puedan permitir que puedan facilitar que nuestros jóvenes

emanciparse a una edad que más o menos esté acorde a la media europea

alternativas a una manera de concebir el último tramo la última etapa de las personas mayores porque hasta ahora la cultura el concepto que hemos tenido en este país y a nivel general ha sido el afrontar

en una serie de condiciones determinadas pero hay experiencias que nos están demostrando que quizá haya otras alternativas que sean más posibilistas

pues de una manera vamos a decir que diferente no por eso menos digna probablemente incluso hasta más digna y en unas posibilidades

a las que tradicionalmente tenemos concebidas por tanto

tenemos experiencias que de alguna manera entendemos como grupo parlamentario que sustenta al gobierno que bien pueden ser impulsadas que bien pueden ser

que bien pueden ser una herramienta para conseguir los objetivos que se plantea este gobierno y que por otra parte de alguna manera también están reflejadas en los ejes estratégicos cinco y seis del plan director de vivienda que si bien no están específicamente mencionados tal y como

experiencias no es menos cierto que sí están de alguna manera reflejadas por tanto creo que ante la imposibilidad que tiene el gobierno de ofrecer una alternativa o de ofrecer o de cubrir al cien por ciento esa demanda que viene

no es menos cierto que la búsqueda de esas nuevas alternativas y la generación también en la sociedad vasca de una nueva cultura al respecto del fomento de

modelos de vivienda de estos nuevos modelos que impulsan y que buscan compartir un espacio que facilite como decía tanto

independencia de los jóvenes a la hora de buscar el abandonar

para afrontar en el caso de las personas mayores el último tramo de su vida entendemos que merece la pena un esfuerzo por parte del gobierno que por otra parte ya

evidentemente dispuesto a hacerlo por tanto tenemos una oportunidad tenemos una oportunidad para impulsar y para crear una nueva cultura

que la redirección de las políticas que apuestan por el alquiler son un buen inicio y creo que apostar por estas nuevas iniciativas

son proyectos que están dando sus primeros pasos creo que son una buena alternativa para intentar testear cuál es la situación cuáles son los problemas cuáles pueden ser también los problemas a la hora de tener un encaje legal

jurídico actual para adaptarlo para mejorarlo para dar cabida a esas alternativas habitacionales y poder impulsarlas en una nueva apuesta de este gobierno por conseguir una sociedad

oportunidades para sus ciudadanos y para sus ciudadanas y para eso que hay algunas cuestiones que son especialmente relevantes y que están recogidas en la enmienda transaccional que hemos pactado todos los grupos enmendantes y es la creación primero de espacios de reflexión de espacios de debate sobre todo que generen esas expectativas que muestren experiencias y que inviten a la sociedad a conocerlas a través del conocimiento se puede generar esa cultura de la que hacía mención

los marcos legales porque los tiempos cambian y por tanto la ley también tiene que adaptarse tiene que adecuarse y tenemos que ver qué encaje legal tienen determinados proyectos en determinadas circunstancias por tanto tenemos que conseguir flexibilidad legal a la hora de buscar ese encaje dentro del marco jurídico que tenemos tenemos que informar es fundamental informar a la sociedad

de nuestros municipios a través de quienes probablemente consigamos esa cercanía con los ciudadanos para poner en marcha esos proyectos porque la tramitación

afecta principalmente a los ayuntamientos y es a través de los ayuntamientos también desde el conocimiento desde la cercanía de la realidad de cada municipio desde donde se pueden impulsar también esos proyectos apoyando por supuesto las iniciativas financieramente ya existen algunas partidas que pudieran

para que estos proyectos sean una realidad y por supuesto también aportando suelo que cada vez es más escaso el suelo de

en el caso del gobierno autonómico pero en el caso de muchos municipios se sigue contando con un número nada desdeñable de suelos de parcelas que pueden estar destinadas incluso también edificios que como hemos mostrado como se ha demostrado

se puede aportar a la hora de poner en marcha

estos proyectos por tanto creo que debemos de felicitarnos no solo por la sintonía que hemos encontrado los diferentes grupos parlamentarios alrededor de esta iniciativa pero sobre todo porque considero que continuamos avanzando no solo para tener herramientas e instrumentos de apoyo a estas iniciativas

siga siendo un ejemplo en políticas de vivienda que den una mayor

y de afrontar el último tramo de la vida a través de proyectos que dignifiquen esos últimos años de nuestros mayores eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna

señora presidenta buenos días a todos pues tal y como señala casi al principio la propuesta la problemática relacionada con la vivienda con el acceso a la vivienda ha sido debatida en muchas ocasiones en esta cámara porque

absolutamente todas las cuestiones pues vemos como en muchos plenos siguen surgiendo problemas problemas que nos tenemos que enfrentar para solucionarlos bien sea como se ha dicho aquí a veces por la dificultad de al acceso a las personas más vulnerables bien por la juventud como también ha dicho el señor becerra

se hace muy tarde en euskadi o bien también por falta de recursos económicos o por personas mayores que están buscando

a veces problemas para personas que no teniendo tanto grado de

que no les permiten acudir a vivienda protegida sin embargo también tiene problemas porque el mercado libre en ocasiones pues los precios son elevados pero

berasaluze no solamente se trata de satisfacer necesidades o de cumplimentar las necesidades que también pero también los deseos

desde las instituciones tampoco podemos es imponer una fórmula determinada y cuando se eligen otras fórmulas de vida para solucionar necesidades como se ha dicho aquí que pueden ser

porque se quiere vivir de otra manera las instituciones tienen que no solamente estar para impulsar sino también en ocasiones para regularlo

garantías a esos nuevos modelos de vivienda que en muchas ocasiones responden a nuevas filosofías de vida este movimiento nace

se ha inventado nada nuevo en los años sesenta setenta en el que los sistemas clásicos entran en crisis y empiezan a desarrollarse otros modelos y otras fórmulas

a buscar alojamientos autónomos con instalaciones comunes y de esa manera nace el cohousing con el paso de los años se empieza ya extender a toda europa portugal italia inglaterra suiza

y en españa la primera iniciativa como tal nace en el año dos mil dos que luego comienza a estar operativa en el año dos mil trece con el centro social de convivencia para mayores de trabensol en torremocha de jarama y que se había inspirado también en cooperativas que existían fuera de españa existen como se ha dicho aquí distintas fórmulas por una parte puede ser la senior cohousing que son grupos de personas mayores o intergeneracional cohousing o también como se nos explicó aquí las cesiones de uso para vivienda

aprueba por unanimidad una iniciativa del partido popular con aportaciones entonces del partido socialista del grupo mixto y de ciudadanos que precisamente estaba referida a esos nuevos modelos de convivencia entre las personas mayores y que nacían como consecuencia

se ha dicho aquí y en dos mil dieciocho por medio del real decreto ciento seis barra dos mil dieciocho el plan estatal de vivienda ya incluye un programa de fomento de viviendas para personas mayores en esta modalidad de cohousing y además se les dan ayudas

cuadrado y es que las experiencias de cohousing han crecido mucho porque por ejemplo en el año dos mil diecisiete

en toda españa y en marzo de dos mil diecinueve se había multiplicado a casi cuatrocientos

treinta y tres iniciativas intergeneracionales y luego otras funcionando otras diecinueve de muy diversa índole como con personas con discapacidad

y que tenían distintos encuadres y distintas necesidades el mapa como vemos ha cambiado radicalmente hay distintas fórmulas y además ha crecido ostensiblemente es verdad ellos lo comentan queda camino por se enfrentan a múltiples dificultades en muchas ocasiones la falta de suelo asequible a veces el desconocimiento del modelo no solamente a veces por parte de las instituciones sino por parte de los propios

por aproximación lo conocía para preparar esta iniciativa pues he ido estudiando

y a veces como decía ese desconocimiento llega a los propios ayuntamientos que cuando se les plantean ideas sobre un terreno determinado a realizar

ocasiones esa falta de conocimiento precisamente lo que crea es desconfianza no entonces yo creo que en ese sentido cuanto más conocimiento se tenga pues

una novedosa pues en ocasiones es difícil dar cobertura jurídica y dar seguridad porque muchas veces no solamente está en el inicio

y de ese nuevo proyecto además que es que

en españa en las distintas comunidades autónomas hay normativa distinta pero incluso tratamiento fiscal distinto a este tipo de viviendas en algunos se les cobran iva en otros no se les cobra entonces

es bueno porque de esa manera pues con más seguridad se genera más confianza en euskadi y lo pudimos ver aquí cuando

comparecieron distintas asociaciones en la comisión pues más o menos se ha producido el mismo proceso y se les han planteado más o menos

prevista precisamente la construcción de una promoción de vivienda en cooperativa para mayores en suelo público y en régimen de alquiler con lo cual vemos ya que las propias instituciones se van implicando en esta cuestión y luego ya hay asociaciones que no están en el ámbito de lo público sino en el tercer sector pero que tienen proyectos interesantes no así pues aquí comparecieron precisamente para plantear esas fórmulas de

para integrar eficiencia y aprovechamiento de los recursos proyectos que venían a diseñar

pero esos deseos no dejan de responder a necesidades que si no las instituciones públicas pues deberían de alguna otra manera satisfacer así por ejemplo

las que comparecieron aquí pues egunsentia nos habló del cohousing senior y vino precisamente a hablar proyecto de vida conectado con un objetivo que es compartido también con la estrategia vasca de envejecimiento que es precisamente el mantener a las personas mayores no solamente viviendo en casa es decir no residencializados sino incluso viviendo en su propio entorno es decir que no cambien tampoco de entorno y a través de este tipo de proyectos pues lo podían conseguir también vinieron desde elkarbidean cuyos objetivos

y promoción de modelos de intervención con personas mayores pero también vinieron desde otros ámbitos no tan relacionados con personas mayores como ametse o abaraxka o también tuvimos experiencias de ayuntamientos como se ha dicho aquí como de rentería y de usurbil y todas ellas vinieron a explicar

a su juicio tenía este modelo dentro del ámbito de la vivienda por una parte permitía acceder a una vivienda digna y duradera y en algunos casos más económicamente que otras fórmulas tanto para jóvenes como para familias y mayores combinando además espacios privados y comunitarios

vinieron a hablarnos también de la ventaja que suponía esa fórmula de cesión de uso que en muchas ocasiones permitía que el que vaya

una hipoteca y que a veces la cantidad mensual que hay que pagar incluso es inferior a los alquileres que por ahí se están pagando suponía también en cierta medida freno a la especulación y pues para

además de una política activa de vivienda también podía suponer una política activa como hemos dicho de personas

salvo que se aporte el suelo pero que incluso a veces también aportando el suelo

la inversión pública en vivienda pero no solamente para las ventajas del modelo en sí sino que también para la propia sociedad y para las instituciones como digo tenían ventaja

dentro de la iniciativa original y que yo creo que ha sido mejorada con la enmienda de transacción que se ha firmado vinieron a plantearnos los mismos problemas que se planteaban en el resto de españa intentando que

soluciones que es verdad que no siempre es fácil porque como decía el señor becerra a veces encajarlo y también se ha dicho aquí encajarlo en la ley

intentar evitar esa confusión administrativa entre el modelo y sus características dar seguridad y cobertura jurídica y crear ese marco

permita facilitar esas actuaciones en el territorio por lo tanto yo creo que desde las instituciones podemos y debemos ayudar y colaborar con esos nuevos modelos incluso buscar desde las instituciones la implantación de nuevos modelos y para ello pues como se propone en la enmienda pues crear espacios de reflexión y compartir experiencias que

positivo también es importante y lo decía antes el asesoramiento y la información porque son modelos novedosos entonces en muchas ocasiones esos recelos que pueden despertar en un principio con

pues se pueden perfectamente eliminar y luego como digo y ese

ayudando a los ayuntamientos para que este tipo de nuevas fórmulas de vivienda no solamente respondan a las necesidades sino también a los deseos
haya seguridad jurídica en su inicio y en su desarrollo muchas gracias eskerrik asko llanos andrea erantzunen txandan

una parte de mi tiempo para compartir isiltasuna mesedez

en labores de salvamento marítimo en campamentos de personas refugiadas o poniendo en marcha redes de acogida y solidaridad por todo euskadi algunas

en segundo lugar si vamos a hablar como hoy de iniciativas parlamentarias en torno a las migraciones creo que es de rigor

el ingente trabajo que ha realizado la compañera de elkarrekin podemos que me ha pasado el testigo en esta cámara tinixara guanche

de cuarenta las iniciativas elaboradas presentadas y defendidas por mi compañera sobre migraciones y personas refugiadas nada menos que el noventa y cinco por ciento de todas las iniciativas que se han tratado en esta institución sobre esta temática en la presente legislatura

son más de cuarenta iniciativas de las que se incluyen comparecencias para abrir el parlamento a las organizaciones sociales a personas expertas y a grandes defensoras de derechos como helena

pero también ocho proposiciones no de ley con medidas concretas en materia de migración

y en siete de las cuales casi su totalidad hemos logrado alcanzar acuerdos en esta cámara

aquel día instamos a garantizar que todas las personas refugiadas que llegan a euskadi puedan acceder a los derechos con independencia de su origen o vía de entrada

más tarde se logró un acuerdo con medidas concretas para facilitar los trámites de nacionalización

luego en mayo de dos mil diecisiete se alcanzó un acuerdo también en relación con la unión europea en la agenda europea de migración se acordó también por unanimidad

inmigración horizonte dos mil veinte además en esta cámara se han alcanzado acuerdos sobre el retorno de las personas emigradas desde euskadi a otros lugares del mundo

se alcanzó un acuerdo con medidas para mejorar la acogida de personas migrantes y refugiadas en mi opinión creo que merece también un reconocimiento reconocimiento al esfuerzo de todos los grupos parlamentarios por alcanzar acuerdos y por encontrar aquello que nos une

es imprescindible impulsar políticas medidas y soluciones concretas más aún en este tiempo que nos ha tocado en el que las extremas derechas

europeo las fuerzas políticas que defendemos la democracia y los derechos humanos tenemos que enviar un mensaje unánime

y en particular a quienes presentan a las presas migrantes como una amenaza por desgracia la falsedad la xenofobia el racismo el clasismo y la inundan cada vez más los discursos y mensajes políticos con el fin de obtener rendimiento

al interior de un centro de niñas y niños extranjeros ante semejante ola de odio cobra aún más importancia que en esta cámara hayamos sido capaces de anteponer

a través de este acuerdo hoy nos volvemos a reafirmar en manifestaciones que ya hemos hecho anteriormente en este parlamento

hoy también este parlamento vuelve a manifestar su preocupación por el rumbo que han tomado las políticas europeas ya en dos mil dieciséis hace tres años

se afirmaba que más de sesenta y cinco millónes de personas en el mundo han tenido que huir en busca de refugio porque les perseguían por diversos motivos

huyendo de la guerra y de otras violaciones de los derechos humanos el proceso de reubicación

estas no son bastantes para la cantidad de personas que están viniendo cuando su vida corre peligro

lamentablemente tres años después esta afirmación sigue plenamente vigente

tenemos que continuar trabajando desde el papel que tenemos en las instituciones para frenar la xenofobia el racismo y la aporofobia que se sustentan las necropolíticas esas que determinan quién tiene importancia y quién no

y este parlamento vuelve a solicitar a las instituciones de la unión europea que reconduzca las políticas en el marco de los derechos humanos y habrá que hacer esa solicitud todas las veces que haga falta

hasta que existan vías seguras y legales para quienes huyan de conflictos violentos y hasta que se amplíe la política de visados asilo y pre detección con el fin último

de las personas migrantes y refugiadas en su tránsito migratorio desde elkarrekin podemos señalamos las deficiencias de la unión europea y también trabajamos para buscar y encontrar soluciones mejoras

es por eso que hemos propuesto y acordado instar al gobierno vasco a seguir desarrollando los servicios y las prestaciones

el sistema vasco de servicios sociales y todos los sistemas de protección así como a realizar las adecuaciones los refuerzos y los ajustes de recursos que sean pertinentes con el fin de facilitar el acceso al empadronamiento y la universalidad de la educación la sanidad

también es necesario seguir avanzando en el desarrollo de las medidas previstas en el quinto plan de actuación en el ámbito de la ciudadanía

pero también en este acuerdo de hoy nos parece especialmente importante

la puesta en marcha de un grupo de personas expertas en materia de extranjería para avanzar en la reflexión y análisis del marco legal que nos permita llegar al máximo de las competencias autonómicas

con el fin de poner en funcionamiento todas las medidas e instrumentos posibles para favorecer la acogida la atención y la integración en definitiva la protección de los derechos humanos de las personas migrantes

y es de justicia solidaridad avanzar en un camino que nos permita ser una sociedad que acoja a quiénes ahora se ven forzadas a salir de su tierra en busca de una vida mejor desde elkarrekin podemos

y para ello seguimos trabajando con propuestas para unas políticas de convivencia que se centren en la igualdad efectiva de derechos que luchen contra el racismo y las discriminaciones y que valoren y cuiden la diversidad y la riqueza

por todo esto hoy celebramos realmente este acuerdo y celebramos que una vez más diversas fuerzas políticas

podido encontrar en la defensa de los derechos humanos eskerrik asko eskerrik asko

quiero mandar un fuerte abrazo a las y los menores del centro

víctimas de la intolerancia y del racismo por fascistas que son

y lo que no es demócrata no se le puede normalizar y estas son las consecuencias pero no pasarán

hay alrededor de setenta millónes de personas desplazadas en el mundo veinticinco millónes de las cuales son personas refugiadas un tercio mujeres

que a pesar de los discursos populistas el ochenta por ciento de esta población está fuera de las fronteras europeas la unión europea y sus estados miembros por un lado

indivisibilidad y la interdependencia de los derechos fundamentales y por otro adoptan políticas que ignoran o violan estos derechos de las personas migrantes el derecho a migrar ius migrandi por ejemplo para razonar la conquista de américa se les niega ahora a quienes se dirigen al norte procedentes del sur migrar es un acto existencial y político el ius migrandi implica un deber de acogida pero esto choca con la soberanía de los estados

violando por tanto sus derechos fundamentales el único propósito de la política europea es cerrar la entrada de personas migrantes y refugiadas

de los recursos del sur que no puede considerarse legitima ni éticamente justificable las políticas de la unión europea sobre migración y asilo empezando por los acuerdos adoptados por los estados de la unión europea y países terceros como turquía supone la negación a derechos fundamentales de las personas y los pueblos migrantes que afectan a su dignidad al definirlas como clandestinas e ilegales y al considerar ilegales actividades de socorro y salvamento marítimo esta misma semana en una carta abierta el presidente de médicos sin fronteras christos christou insta a la unión europea

en grecia personas solicitantes que están en diferentes campos de refugiadas y refugiados en condiciones deplorables y además fruto precisamente de acuerdos criminales como el de la unión europea y turquía la ausencia de predisposición de canales legales y seguros para llegar al territorio europeo

a las mafias libias lo que está provocando muertes deportaciones desaparición de personas encarcelamientos arbitrarios torturas violencia sexual y esclavitud en general con una persecución sistemática a la población migrante todo un crimen de lesa humanidad de esta forma

decenas de miles de personas que esperaban llegar a un lugar que imaginaban seguro y acogedor entre las conclusiones del tribunal permanente de los pueblos un tribunal ético

establecían que las prácticas de la unión europea y los estados que la conforman en cuanto a asilo e inmigración constituyen en su conjunto una completa negación de derechos fundamentales de las personas migrantes

suponiendo por tanto auténticos crímenes de lesa humanidad que además exige una responsabilidad directa a la unión europea y a sus estados por negar operaciones de rescate por haber sido cómplices de homicidios torturas malos tratos y por tanto en este caso la unión europea la obligación de adoptar políticas que vayan en primer lugar a atajar las causas de esas migraciones causas socioeconómicas causas belicistas y causas que están precisamente en manos de la propia unión europea a los estados miembros y que también van desde lo local

a petición de este grupo parlamentario en la pasada legislatura rechazó este parlamento de manera unánime ese criminal acuerdo y otros acuerdos como el de italia y libia

humanos y asimismo en posturas como las de naciones unidas hay que poner fin a cada acción de hostilidad y criminalización en contra de la labor que realizan las ong de salvamento marítimo y humanitario

prácticas que alimentan la xenofobia y el odio y que dan lugar a una situación de entorno hostil empezando desde el ámbito local

hemos firmado una enmienda transaccional con el partido nacionalista vasco y el partido socialista para señalar la responsabilidad de la unión europea por todo lo comentado anteriormente también

en una acogida integral en términos de universalidad resaltando la importancia en este caso de desarrollar en su integridad una ley de servicios sociales para garantizar todos los derechos para todas las personas sin exclusión esto es muy importante resaltarlo porque aunque hemos acordado pactos importantes como el pacto por la inmigración al que nos hemos adherido en araba vizcaya y guipúzcoa sigue siendo la sociedad civil

y esto tendría que llevarlo a cabo el gobierno vasco y es por ello que somos críticas en algunos aspectos y seremos exigentes al respecto esta misma semana sos arrazakeria o la red ciudadana de acogida ha mostrado su rechazo

más importante que escenificar un pacto que es muy importante pero más importante que esto es cumplir con los deberes de acoger de un modo integral facilitar el empadronamiento y contar con un sistema de servicios sociales garantista en este sentido pedimos una vez más desde esta al gobierno la retirada de la ley de reforma de la renta de garantía de ingresos el revertir los recortes que en esta materia se llevan a cabo porque afectan a decenas de miles de personas y a los colectivos en su defecto más vulnerables o para defender en este caso como lo hemos hecho en esta propuesta

al desarrollo para reivindicar y defender el desarrollo humano sostenible en las poblaciones de origen esto también tiene que ir para el propio gobierno vasco y es momento de cumplir también con la ley vasca de cooperación y finalmente ponemos en valor y así lo hemos expresado en esta propuesta

en su defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas tanto a nivel local en nuestras ciudades pueblos y barrios como

que ha rescatado a pesar de las múltiples trabas a setenta y ocho personas

de nuevo lehendakari consejera señorías bien lo cierto es que sí que es cierto sí que es verdad que hemos hablado en muchas ocasiones

muchas iniciativas y de muchas propuestas de migración y de las personas refugiadas y de los inmigrantes no y los inmigrantes y lo hacemos una vez más no en la semana de la firma del pacto social vasco

desde luego las dos iniciativas han cambiado mucho las dos iniciativas han cambiado mucho desde la formulación primera hasta la firma de la enmienda de transacción han cambiado no sé si será consecuencia de lo vivido también esta semana en relación con

pero la primera la del grupo elkarrekin podemos se hablaba de un sistema vasco de acogida

no podemos andar desde nuestro punto de vista con excesivos localismos es decir hay que hacer un análisis y un planteamiento que es una de las cuestiones que nosotros

social vasco para la migración no es una cuestión

analicemos nosotros solos y que nosotros solos la califiquemos y que nosotros

de una manera global en el ámbito fundamentalmente de españa del estado hay que hablarlo también conjuntamente con españa dentro de la unión europea tratar de modificar las políticas públicas que quizá no funcionan pero hacerlo en ese marco no esa excesiva regionalización o localización

necesarios no la otra iniciativa

euskal herria bildu partía de graves atribución de graves responsabilidades a la unión europea responsabilidad

de las personas refugiadas las denuncias de las políticas de la unión europea en lo que era el texto de esa moción de esa iniciativa de esa proposición no ley también

de esas iniciativas desde luego que no podíamos compartir ni compartimos esa atribución de responsabilidades

a las políticas de la unión europea las consensuadas y las comunes está bien claro que todo no funcionará bien y que hay problemas y que ha habido disfunciones en un fenómeno tan masivo y tan brutal como ha sido a veces determinados movimientos de personas no y en ese sentido

entendemos esta política dentro de un marco de cooperación

en todas las iniciativas y en todas las propuestas que se hagan desde esta cámara y echamos de menos desde luego ese planteamiento aquí nosotros en nuestras dos enmiendas de totalidad queríamos además cuestiones que también hemos reclamado dentro de la insuficiencia o de las carencias del pacto social vasco para la inmigración

a la realización de un informe de necesidades de cara a disponer de instrumentos estables pero un informe de necesidades tenemos que saber tiene que haber un diagnóstico tenemos que saber de verdad

del fenómeno migratorio las personas de dónde vienen qué vienen con qué fines transitan se quedan van y vienen es decir

decir hay muchas cuestiones que tienen que tener un diagnóstico que no se tiene que no se tiene por parte de las instituciones que no lo tiene el pacto social vasco para la migración y lo hemos echado de menos y por eso mismo no lo hemos

en relación con esta cuestión y ese informe que nosotros pedíamos que vendría al parlamento y al resto de instituciones bueno que tendría medidas oportunas pero cómo habría que hacerlas

con el resto de administraciones competentes es decir vuelvo a decir y vuelvo a reclamar la presencia de la actuación conjunta

y y por ende de la unión europea en relación con esta cuestión también en la otra enmienda de totalidad en relación con la otra iniciativa

de que nosotros al revés de la desconfianza nosotros confiamos en la unión europea

y queríamos manifestar y queríamos poner en valor que el parlamento vasco confía en los esfuerzos de las distintas instituciones de la unión europea del parlamento el consejo comisión y órganos administrativos dependientes ahí no impera el populismo y no y esas políticas que efectivamente xenófobas o racistas que imperan en algunos dirigentes políticos no pero

en esa unidad de acción en relación con lo que es la unión europea

medidas de apoyo también lo hacíamos así no para la integridad de las personas migrantes y refugiadas apoyando planes de cooperación al desarrollo en ese marco de actuación no europeo

importante y eso tendría que hacer también una iniciativa como esta no fijar ese marco

también se tiene que hablar hay que neutralizar con la colaboración internacional la actividad criminal

que trafican con personas hemos echado también de menos un planteamiento en ese sentido o sea

del sufrimiento que desde luego que tienen esas personas y en ese sentido las dos iniciativas que se habían planteado nosotros recogíamos nuestras enmiendas

es decir queremos nosotros desde luego políticas públicas que consideren varias cosas en relación con el fenómeno de la migración

la acogida en las mejores condiciones el respeto a los derechos humanos

y lo tenemos que decir así porque lo tenemos que defender así porque es una cuestión que a la sociedad también le preocupa

que consideren varias cosas como el control y la inmigración ordenada y legal es para nosotros esencial en estos textos no hay distinción entre la inmigración ordenada

pero está ahí hay normas que cumplir hay textos jurídicos hay marco jurídico en el que tenemos que desarrollar las políticas de migración también y no existen en estos textos

en este tipo de enmiendas y nosotros sí hay leyes que cumplir leyes europeas leyes estatales leyes

en relación con el control la inmigración ordenada y legal esa lucha contra las mafias que nosotros echamos de menos

que se tiene que producir y la coordinación

la coordinación con las administraciones la administración

de inmigración no solo un planteamiento regional es decir eso para nosotros

es esencial la iniciativa en definitiva como decía antes

entre la inmigración ordenada y esas situaciones caóticas a veces que causan problemas que preocupan a los ciudadanos y a las ciudadanas en algunos sitios en muchos sitios pero preocupan y

las cuestiones tienen que venir con un marchamo de legalidad que favorezca independientemente de que de que si no ocurre así también haya que tomar medidas de acogimiento de respeto de defensa de los derechos humanos y de defensa de la persona por supuesto que sí pero en cualquier caso hay que plantear y

un tanto distinto al que últimamente estamos viendo en esta cuestión hay que distinguir y la iniciativa

tampoco lo hace el pacto social vasco para la migración donde nosotros establecíamos y veíamos una serie de carencias en relación con

en el pacto y una serie de faltas de estrategia

esa descripción que nos sirva a todos para seguir valorando

en relación con los propósitos de tránsito o no o de estabilidad

en españa y en la unión europea leyes que afectan en relación con la ordenación

también es cierto no cabe en nuestra sociedad ninguna forma de xenofobia no cabe ninguna forma de racismo o discursos que

y de odio eso desde luego no cabe en nuestra sociedad pero qué tenemos que hacer estamos en la unión europea y estamos en españa y los vascos tenemos que colaborar

y con el gobierno de la unión europea cumplir la ley y hacer análisis y diagnósticos
que no se han hecho ni en esta iniciativa ni en el pacto social vasco por la inmigración muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

migrantes y refugiadas hemos tratado recientemente

se hizo aproximadamente hace dos meses en ese momento hubo también bastante sintonía bastante acuerdo entre

entre cuatro grupos y que también el grupo popular aunque no lo firmo terminó con una posición de abstención y en aquella transaccional

que son respetuosas con los derechos humanos se compartía la apuesta en las políticas públicas migratorias que se realizan desde una perspectiva integral y transversal

con las instituciones y entidades del tercer sector para garantizar una atención adecuada a la población migrante y refugiada al desarrollo del quinto plan de actuación en el ámbito de la ciudadanía

en el plan de convivencia y derechos humanos dos mil diecisiete dos mil veinte a que a través de ikuspegi en el observatorio vasco de inmigración se realice un estudio sobre necesidades de las personas migrantes solicitantes de asilo y refugiadas en la sociedad vasca ya que ese avance en la identificación e implementación de mecanismos

dentro de las competencias de las instituciones vascas mediante una evaluación participada por las personas migrantes y refugiadas protagonistas de los procesos de inclusión

de prosperidad y seguridad tanto para ellos como para sus familias nuestro país ha sido según las condiciones del momento también origen y destino de migrantes

pero también constituyen un desafío que entraña a su vez una oportunidad

la euskadi de hoy y la euskadi de mañana va a ser una sociedad diversa y plural la diversidad forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad colectiva

al inmigrante que se traduce en discursos y en políticas xenófobas

enérgicamente tenemos que abordar la inmigración desde la igualdad y el principio de la no discriminación nos ha de inspirar la declaración universal siempre de los derechos humanos pero este reconocimiento de la no discriminación ha de ir acompañado necesariamente de prácticas y actitudes que favorezcan la igualdad discriminación desde el grupo socialista siempre hemos defendido un pacto social por la migración

provoque el impulso de medidas dirigidas a facilitar el acceso de las personas inmigrantes a los servicios públicos en condiciones de igualdad

sanitarios sociales de vivienda empleo y de justicia que impulse la sensibilización sobre los valores positivos

inmigrante y también somos la sociedad que somos porque la euskadi de hoy lo es porque ha vivido y se ha construido con el trabajo y el esfuerzo de miles de personas

igualmente un futuro mejor y que ahora también constituyen la actual ciudadanía vasca una ciudadanía solidaria comprometida respetuosa plural y diversa debemos de hablar de derechos debemos de hablar de deberes porque el respectivo ejercicio de asunción de unos y otros es la prueba fehaciente de la igualdad

donde se ha dado la oportunidad de efectuar aportaciones a todos los grupos políticos de esta cámara todos los grupos conocemos el inicio de la elaboración desde

y el sábado pasado se planteó con presencia del lehendakari ante las diferentes instituciones diputaciones y ayuntamientos

en la fase de adhesión de las diferentes instituciones a los principios y acciones recogidos en el mismo es un paso importante que favorecerá una mayor coordinación entre todas las entidades públicas y privadas que se adhieran al mismo

así que para el grupo socialista todas las iniciativas que se propongan para mejorar la atención y la respuesta a esta realidad a la realidad de estas personas no solo son necesarias sino que también son una obligación a asumir por las sociedades democráticas se ha llegado como se ha comentado ya a una transacción en esa transacción se rechaza que

se plantea una denuncia sobre los discursos y los actos institucionales xenófobos y de odio que se vienen produciendo en europa se alerta sobre la falta de una política migratoria común en la unión europea no tanto

se insta a reforzar las actuaciones del pacto social vasco para la migración se insta a avanzar en medidas que den mejor respuesta a la crisis humanitaria que sufren las personas

de las personas migrantes y refugiadas se remarca la importancia de la cooperación internacional en el desarrollo económico y social con otros países empobrecidos se reclama a la unión europea vías seguras y legales para quienes huyen de conflictos violentos y hostigamientos y se reconoce la labor de quienes se implican solidariamente

y refugiadas ojalá que este acuerdo esta intención este planteamiento que siempre pretende dar un paso más lo dé

en la solidaridad con esta situación en la que

probablemente a estas alturas la mayor vergüenza de los demócrata la mayor vergüenza de nuestra civilización

y es que tengamos a millónes de migrantes a millónes de refugiados de personas que están huyendo de la guerra y de la vulneración de los derechos humanos del empobrecimiento y que los tengamos deambulando por el mundo haciendo

pero dificultando mucho y generando muchas dificultades para que tengan el tratamiento adecuado que se merece a sociedades democráticamente avanzadas

goraka doan aniztasun kulturala errespetatuz eta bizikidetza klabe interkulturalean sustatuz basándonos en ese objetivo como decía el señor ruiz instamos en esta transacción al gobierno vasco a seguir desarrollando los servicios y las prestaciones

y todos los sistemas de protección así como a realizar adecuaciones refuerzos y los ajustes de recursos que sean pertinentes con el fin como decía de promover la máxima extensión posible

con independencia de la nacionalidad e impulsar la universalidad de la educación la sanidad o las prestaciones sociales básicas honegaz batera plan horretan oinarrituz

mahaiburu andrea nire eserlekutik un par de reflexiones simplemente en primer lugar el señor barrio decía que confía en esta unión europea nosotras no confiamos en esta unión europea tal y como está ahora mismo una unión europea que está dejando morir a treinta y seis mil personas en aguas del mediterráneo

una unión europea que está poniendo vallas acuchilladas allí donde puede o que realiza

manera con la turquía de erdogan por ejemplo que está exterminando al pueblo kurdo no confiamos en esta unión europea confiamos en la unión europea de los pueblos de los derechos humanos la unión europea de los principios de ciudadanía global y solidaridad entre los pueblos y por ello estamos en europa para reivindicar

esos principios que tan necesarios son hoy más que nunca es muy importante en temas como estos y además

de persona migrante y de conocer de primera mano a mi alrededor como es la situación de las personas que ya viven aquí y de las dificultades a las que se enfrentan diariamente pero también porque no tiene ningún tipo de comparación con las personas refugiadas que todo tipo de vulneraciones de derechos humanos intentan llegar hasta nuestras ciudades hasta nuestros pueblos hasta nuestros barrios para intentar tener un futuro mejor

íntegro de los derechos humanos para que todas las personas tengan los mismos derechos sin exclusión eskerrik asko eskerrik asko

barrio jauna bertatik zurea da hitza sí brevísimamente con su permiso desde el escaño señora presidenta simplemente para decir

se puede calificar que alguna no ha sido acertada o eficaz pero se puede confiar

en que la unión europea es un marco de referencia en relación con los derechos humanos con las libertades

entendemos que eso es un elemento fundamental es decir hablar de la criminalización de la unión europea hablar de sus responsabilidades hablar y no hablar ni en un momento de la actitud criminal de esas mafias que arrastran a las personas a la muerte

no se puede decir eso nosotros confiamos desde luego en marcos de acción interinstitucional de marcos de acción y de actuación amplios en fenómenos como este es decir fenómenos

inmigración cuando es ilegal cuando es desordenada causan problemas en la sociedad entonces hay que analizarlo hay que analizarlo porque les preocupa a los ciudadanos y a las ciudadanas y en ese sentido nosotros nos queremos mover en los marcos nos queremos en el marco español

y eso lo hemos hecho en falta en el pacto social para la inmigración y en esta declaración que ustedes han firmado muchas gracias